gracias señora presidenta buenos días lehendakari

señorías buenos días desde luego no emplearé

sobre la que el gobierno también ha dado un informe favorable en relación con la toma en consideración mi grupo presenta esta iniciativa creo que entendiendo

de enriquecer algo básico en el sistema educativo esencial importante como

escolar de euskadi después de haber tenido contactos

hemos detectado una insuficiencia hemos podido detectar ese déficit

una ausencia en la composición en el consejo escolar de euskadi las cooperativas de enseñanza no están representadas no forman parte del consejo escolar de euskadi de los consejos escolares de euskadi y sin embargo

las características esenciales que tienen que ver con la educación y con el propio elemento que representa la economía social pues es muy importante

sin ir más lejos tenemos que recordar que la oferta educativa cooperativa en el país vasco es un treinta y seis por ciento de la oferta de la red concertada y es

no universitario es decir pública y concertada es decir datos muy relevantes en relación

situación hemos recurrido hemos valorado datos que se nos han facilitado hemos estado en contacto con asociaciones agrupaciones de cooperativas de enseñanza en concreto recientemente también hemos podido disponer de datos de erkide irakaskuntza

que se constituye como ente representativo de los centros de enseñanza de euskadi con titularidad cooperativa dentro de erkide la federación de cooperativas de trabajo asociado consumo y crédito de euskadi

relevantes y hay un trabajo muy importante tanto en erkide

en el seño fundamentalmente de las cooperativas de enseñanza de las asociadas

en las distintas cooperativas y en los distintos ámbitos y asociaciones que agrupan a las cooperativas desde mil novecientos noventa se lleva trabajando

y actualmente se agrupa en un ámbito como este a ochenta y dos cooperativas de enseñanza dentro de diferentes federaciones diferentes asociaciones de ikastolas

y cooperativas que no forman parte de asociación alguna o sea dentro entramado muy importante de actuación en relación con las cooperativas de enseñanza variopintas diversas pero todas dentro de lo que es el concepto

a la enseñanza aplicado a la educación de los jóvenes algo muy importante según los datos también de los que disponemos el reparto por territorios históricos de cooperativas de enseñanza

vuelvo a decir los datos más relevantes o los federados que son los que más claros son es que son

por modalidad o tipo de cooperativa cooperativas de padres y de madres cincuenta cooperativas integrales veintiuno cooperativas de trabajadores once en ese sentido podemos decir bueno que esas ochenta y dos cooperativas tienen un total

ochocientos cuarenta y siete alumnos y alumnas un dato

un total de seis mil doscientos setenta y seis puestos de trabajo

dato muy relevante en relación con el sector educativo

el dato que decía antes representando un treinta y seis por ciento de la red concertada del país vasco y

además socios padres de cooperativas de enseñanza hay

estamos hablando de cuestiones relevantes importantes y que yo creo que es necesario valorar en lo que es la iniciativa que hemos presentado que es la participación de las cooperativas de enseñanza dentro del consejo escolar de euskadi el consejo escolar de euskadi

es órgano de participación de los sectores sociales implicados en la programación general de enseñanza no universitaria y de consulta y asesoramiento respecto de la normativa que haya de ser propuesta por el gobierno vasco en el ámbito educativo es un factor un órgano

eso es algo que hay que valorar cada día hablamos más de transparencia hablamos más de participación y eso las cooperativas estas fórmulas de economía social que entroncan con la educación

ser protagonistas en esa participación que luego lleve al gobierno vasco a tomar las mejores decisiones

la comunidad educativa el profesorado de enseñanza no universitaria los padres y madres los alumnos

centros docentes privados universidad del país vasco sindicatos de trabajadores organizaciones patronales administración

administración local colegio de doctores y licenciados colectivos pedagógicos consejo de la juventud de euskadi

la representación de la economía social en el ámbito educativo que vuelvo a decir lo hemos visto antes cualitativamente es muy relevante es muy importante y que debe de ocupar un puesto desde luego un puesto que va a ser constructivo no me cabe ninguna duda en relación con la

el camino en el ámbito educativo y está claro que las cooperativas de enseñanza faltan el pleno está formado por cuarenta y seis vocales

en ese sentido hemos detectado esa carencia esa insuficiencia y desde luego yo creo que este parlamento bien puede

para completar esa ausencia esa insuficiencia y por eso hemos presentado la proposición de ley para este debate y para su posterior confirmación como ley en relación con la modificación de la ley trece barra mil novecientos ochenta y ocho de veintiocho de octubre de consejos escolares de euskadi la ley

en esta legislatura se modificará o se cambiará o habrá una ley nueva pero que

en próximas modificaciones son cooperativas de enseñanza las que desarrollan actividades docentes en sus distintos niveles etapas ciclos grados y modalidades en cualquier rama del saber o de la formación

así como prestar servicios escolares y complementarios y cuantos faciliten las actividades docentes es decir ya vemos que las cooperativas de enseñanza
están reguladas por la ley están definidas por la ley isiltasuna mesedez gracias

el nivel de implantación además un nivel de implantación que con el tiempo va aumentando o sea que en ese sentido

por otro lado hablaba de la ley de cooperativas ahora tendremos que hablar de la ley de

modificar a través de esta ley esa ley de consejos escolares

regula la participación social en la programación general de la enseñanza precisamente en los consejos escolares de euskadi nuestra participación en el sistema educativo

es una necesidad ineludible en una sociedad democrática como la de nuestros días

constitucional está claro que poco más hay que decir es decir yo creo que está plenamente justificada la modificación de la ley en relación con la participación de las cooperativas de enseñanza el artículo siete de esa ley el consejo escolar de euskadi es el órgano superior de participación de los sectores sociales implicados en la programación general de la enseñanza no universitaria y de consulta y asesoramiento respecto de los proyectos de ley disposiciones generales y reglamentos que hayan de ser propuestos o dictados por el gobierno vasco en los aspectos

y el cooperativismo forma parte troncal de la economía social y el cooperativismo y economía social se conectan perfectamente con la educación y con la enseñanza

más que ver la experiencia vasca en relación con este tema y lo hacen

con el resto de la enseñanza del factor educativo en este país

conexión entre la enseñanza y el cooperativismo en esta tierra y por eso hemos presentado un texto articulado

en el que se añade un nuevo guión al artículo diez de la ley

con el siguiente tenor literalun representante de las cooperativas de enseñanza es decir para formar parte del consejo

y un representante de las cooperativas de enseñanza del territorio en relación con los consejos escolares de euskadi

es claro que la oportunidad y además forma parte de lo que han sido nuestros contactos y seguro que el de sus señorías con

que trabajan o que forman parte de las asociaciones o de las propias cooperativas de enseñanza seguramente que habrán visto una oportunidad en esta iniciativa

el gobierno vemos que por acuerdo del consejo de gobierno

que plantea la siguiente iniciativa

está claro que asume la necesidad de esta reforma

por eso mismo como hacemos nosotros la relevancia de los centros docentes privados que funcionan en régimen de cooperativa ha sido puesta de manifiesta en el ámbito educativo y la proposición de ley permite

de las mencionadas cooperativas de enseñanza de los consejos escolares esta es la cuestión esperemos que la tramitación de la ley sea también

yo creo que podemos debatir de una manera intensa y que la presencia de la comisión correspondiente estimule y dinamice el debate muchas gracias

bien hoy tratamos la proposición de ley de modificación de la ley tres barra mil novecientos ochenta y ocho

a la que votaremos a favor es una ley por la que se crearon los órganos de consulta participación y asesoramiento en la programación de la enseñanza no universitaria esta ley configuró el consejo siendo responsables en aquel momento

y se configuró el consejo escolar de euskadi como digo como el superior órgano consultivo de participación de los sectores sociales remitiendo un posterior desarrollo reglamentario una vez establecida su composición el consejo escolar

sorteó todas las dificultades que ha de atravesar cualquier órgano desde su creación hasta su implantación definitiva

informando a la administración de todo lo que era preceptivo y fijando criterio como órgano independiente y plural en aspectos relacionados con el estado de la educación en el país vasco suponemos que el consejo escolar de euskadi ha cumplido con sus obligaciones

que es su tarea esencial la de configurarse como referencia obligada independiente y plural

y de participación de los sectores sociales este órgano está compuesto por una función principal y esa es la de participación la de todos los sectores de la comunidad educativa que puedan contribuir y mejorar nuestro sistema educativo y está compuesto por una representación

profesores y madres y alumnos padres madres y alumnos y por otro lado

como es la propia administración y por otro lado los representantes sindicales y por ello votamos a favor de esta proposición de ley

y por este mismo motivo nos parece adecuado y además conveniente la inclusión de un representante de las cooperativas de enseñanza en la representación de este órgano

y para que su conocimiento sus aportaciones y sus propuestas ayuden a mejorar el sistema educativo vasco

la participación en sí misma ya es un valor democrático

de todos los sistemas educativos europeos la participación por lo tanto es necesaria y un consejo escolar que se rija por la autonomía de criterio que sea lo suficientemente autónomo plural e independiente asimismo resulta muy oportuna esta modificación para mejorar la ley vigente se gana en actualización

porque la ley debe regular el derecho a la participación y a la responsabilidad de las distintas piezas del sistema educativo

y componer la participación de la sociedad y de los colectivos sociales en esta corresponsabilidad por el funcionamiento de todo el sistema educativo y si tenemos instrumentos como este y se pueden mejorar lo que hay que hacer es aprovecharse de ellos y ponerlos

real y activa de la comunidad educativa en los asuntos que directamente le competen debería de ser uno de los temas prioritarios prioritarios

realmente la integración de los sectores implicados en un órgano superior de participación asegura una participación real activa y efectiva

y más importante aún si cabe de qué tipo de participación estamos hablando

la verdadera clave es hacer a la ciudadanía partícipe del proceso

hacer a los y las representantes del consejo escolar partícipes activas bukatzeko bakarrik esan nahi dut elkarrekin podemosek

del movimiento cooperativo que nos acompañan hoy en este pleno y

también con brevedad esta segunda iniciativa

de todos los grupos de la anterior proposición de ley

también en el sentido de la anterior iniciativa también nuestro grupo también en el contacto que hemos podido mantener con el sector

lo constructivo la posibilidad de completar la posibilidad de enriquecer

cuando hablamos de transformación competitiva o

estamos también hablando de decenas de iniciativas de decenas de empresas de economía social que tienen en la transformación competitiva que tienen en la innovación

que tienen en la producción económica que tienen en la creación de empleo su característica principal todos los conocemos todos conocemos esos ejemplos de empresas

en esta tierra en este país que precisamente esas son las claves la transformación competitiva y esos ámbitos de desarrollo tecnológico y de innovación y de investigación

por ejemplo también hay que seguir dando datos brevemente en relación con las cooperativas de trabajo asociado según las últimas información de industria construcción servicios que entroncan perfectamente con esa transformación competitiva tiene muchos empleos tiene decenas de miles de empleos dedicados en esas cooperativas

además de las propias cooperativas y de esas características principales en relación con la transformación competitiva hay que sumar también las sociedades

al abrigo de la definición de economía social de la ley cinco barra dos mil once son magnitudes son cantidades en cuanto a la implantación a la creación de empleo en ese sentido a parte del trabajo por la innovación el trabajo por la producción

en cuanto a la implantación en la creación de empleo que además tenemos que ver

autoridad también lo que puede ser un consejo de administración que habla sobre los temas y que decide sobre los temas de política industrial han aguantado bien la crisis fundamentalmente no hay hace poco lo estábamos comentando también en relación con una iniciativa que se presentaba en este parlamento futura comunicación del gobierno sobre economía social han aguantado bien la crisis muchas de estas empresas de carácter cooperativo o de sociedades laborales o alguna otra de las fórmulas de economía social y además siguen aguantándola o los efectos

económicas industriales empresariales o sea que en ese sentido entendemos que se va por buen camino además se calcula son datos también

de sociedades laborales dice que en dos mil veinte habrá mil sociedades laborales lo decía recientemente en alguno de sus informes eso es muy importante además las sociedades laborales ya sabemos que entroncan muy bien también con ese factor

hemos podido detectar también que existe una posibilidad fruto de ese análisis de cómo está el sector de cómo está evolucionando de cómo está funcionando lo veíamos también

informe del observatorio vasco de economía social pero hemos podido detectar que existe una posibilidad de mejorar la composición

administración de la sociedad para la transformación competitiva hemos visto también que podía existir una ausencia una laguna y en ese sentido hemos planteado

también por recordarlo como hacía antes con las cooperativas de enseñanza

la transformación competitiva spri el grupo spri es la agencia de desarrollo empresarial del gobierno vasco con vocación

empresarial de euskadi tiene como objetivo dar apoyo e impulso a las empresas vascas

perfectamente con los modelos cooperativos o con los modelos de

con la sociedad cooperativa pequeña es decir dimensiones grandes

grandes potentes y pequeñas

con la economía social y con las empresas y con las iniciativas

en lo que tiene que ser el análisis que la sociedad para la transformación competitiva desarrolla qué

ser una referencia en europa como institución pública para la transformación competitiva del tejido empresarial bueno pues también algo que entronca con las experiencias cooperativas o de las sociedades laborales que funcionan en esta tierra ligadas a la innovación a la creación de empleo a la producción industrial al crecimiento económico visión del grupo spri pues apoyar e impulsar

colaborando con ello a la generación de riqueza en euskadi a la mejora de bienestar de su ciudadanía mediante un desarrollo humano sostenible en el ámbito de la política de promoción económica del gobierno vasco pues algo que de una manera esencial se liga también a lo que hemos visto una experiencia importante y potente que ha aguantado bien la crisis y que desde luego se tiene que ir desarrollando ahora esperemos además que esos números

producción de las empresas de economía social crezca en un periodo de

liga también la vocación de la spri su visión en relación con las empresas y su misión

en ese sentido a la vista del consejo de administración hemos detectado que el consejo de administración tiene sus representantes de spri tiene sus representantes del gobierno vasco el departamento de las direcciones

de las diputaciones forales tiene sus representantes de kutxabank tiene sus representantes de confebask tiene sus representantes de la cámara de comercio de la red de parques tecnológicos

hemos visto y hemos detectado la esencia de un representante de la economía social como factor empresarial

esas cuestiones a las que se dedica spri bueno y en ese sentido y por no extenderme mucho más hemos presentado la proposición de ley que todos ustedes conocen de modificación de la ley cinco barra mil novecientos ochenta y uno de diez junio sobre creación de la sociedad

llamada sociedad para la transformación competitiva en su momento el pleno del parlamento vasco en una sesión celebrada el quince de octubre de dos mil diez aprobó una proposición no de ley relativa a la participación del movimiento

al conjunto de la economía social una vez que después del dos mil diez en dos mil once por ley del congreso de los diputados la economía social ya ha sido definida pues decía lo siguiente

del movimiento de la economía social los órganos de consulta y participación de la economía vasca esa es la participación en los órganos de consulta de la economía vasca el parlamento vasco valorando de forma muy positiva la

de euskadi insta a las instituciones públicas vascas a profundizar en el reconocimiento del movimiento cooperativo y de la economía social

en los órganos e instituciones que articulan las políticas sociales

es el sitio indicado también para que

en relación con la interlocución con el movimiento de la economía social a la hora de abordar esas cuestiones que ya hemos descrito antes de lo que significa spri

es incuestionable ahí están los datos yo no los voy a repetir lo hemos

de la economía social o de las cooperativas de la economía social depende de quien haga esos informes en el tejido

es un entramado económico organizado es un entramado económico estratégico es un

y tiene retrocesos pero en cualquier caso es un entramado que objetivamente camina con pasos firmes en relación

con el desarrollo económico con el paraguas además de muchas cuestiones importantes de lo que estamos hablando con el paraguas en muchos aspectos exitoso

del sentido social de la producción económica el elemento fundamental que no se nos puede olvidar de esa responsabilidad social empresarial

perfectamente siempre mejorable pero también

universidad como elemento fundamental al tener también esa cuestión sobre la mesa y al estar perfectamente conectada la economía social con la universidad y en el caso nuestro con las tres universidades tenemos que ver cómo la economía social está ligada a la universidad del país vasco a través del instituto gezki está ligada a la universidad de deusto a través del

hay más factor todavía además sustancia gris para aportar

alrededor del seis por ciento del pib las cooperativas es un dato relevante de la comunidad autónoma vasca

desde nuestro punto de vista y por eso lo hemos planteado que el gobierno vasco

y por eso nosotros hemos presentado la reforma en un artículo único

nosotros décimos que se nombre por parte del gobierno vasco que los miembros del consejo de administración de la sociedad

correspondan a la parte del capital social suscrito por la comunidad autónoma sean nombrado en su caso

a la comisión de economía hacienda y presupuestos de esta cámara entre los miembros del consejo de administración se
incluya un representante de la economía social nosotros hablábamos también barrio jauna mesedez isiltasuna

lo importante es la designación de ese miembro de la economía social hablábamos de un comité asesor compuesto por personas de reconocida solvencia y capacidad profesional previa notificación al parlamento eso es una cuestión que incluimos nosotros como elemento de reflexión entroncaba bien pero bueno se podrá debatir en lo que es el desarrollo de esta iniciativa

favorable en términos generales por parte del gobierno y agradecemos ese criterio favorable

yo creo que será fácil encontrar alguna postura cercana si el objetivo de la representación se consigue es decir

ya se reconocen algunas objeciones en relación con confebask en relación con las políticas industriales que actualmente desarrolla la spri desde luego no son objeciones insalvables todo al revés yo creo que se consolidan si hacemos una buena negociación en relación con ese representación

para la transformación competitiva debe ser lo más práctico y operativo posible eso

que sea lo más práctico lo más operativo posible y por eso pensamos que si hay elementos de autoridad que completan

será desde luego más dinámico ese consejo de administración por eso mismo

está reconocido y por eso lo queremos trasladar a esa reforma de la ley de la sociedad

un debate en relación con el comité asesor vinculada a la misma no tenemos ningún inconveniente lo importante para nosotros es la representación

en mi intervención muchas gracias eskerrik asko barrio jauna aurkako

presidenta buenos días los socialistas vascos vamos a votar a favor de la proposición de ley de modificación de la ley cinco barra mil novecientos ochenta y uno de diez de junio de creación de la

primero porque entendemos que es un requerimiento del propio ámbito de la economía social y que resulta coherente con el acuerdo que adoptamos en esta misma cámara

a profundizar en el reconocimiento del movimiento cooperativo vasco y de la economía social en general dando los pasos necesarios para lograr su presencia en los órganos

que articulan las políticas sociales y económicas de euskadi en segundo lugar vamos a votar a favor porque el debate en la ponencia ajustará los términos de la modificación de dicha ley pero en esta primera instancia sí pretendemos dejar claro los socialistas vascos las características de la economía social vasca respecto a la economía

en las áreas principales de intervención de la sociedad para la transformación competitiva porque si bien es cierto que la spri se constituyó en mil novecientos ochenta y uno como uno de los principales instrumentos

en relación sobre todo a la promoción y reconversión de la industria vasca

para el mantenimiento y la creación de empleo no es menos cierto que hay tres características principales de la economía social vasca que son de especial interés con relación a las acciones

para la transformación competitiva como son la innovación como un pilar básico de competitividad la apuesta por la innovación es un riesgo y una apuesta comparativamente más consolidada entre las empresas de la economía social que en el conjunto de la economía vasca

la proporción del colectivo empresarial adscrito a la economía social que realizaba actividades de innovación se le daba a cuatro coma seis puntos porcentuales por encima

la innovación tiene un efecto positivo sobre el empleo que resulta similar en la economía social y en el conjunto del sistema económico de euskadi y la actuación innovadora revierte comparativamente de forma más favorable en el empleo de la economía social y en especial en lo relativo al empleo

otra característica importante es que a pesar de las dificultades a las que se enfrentan la facturación y el empleo el grado de apertura a los mercados exteriores continúa siendo una apuesta clara por parte del tejido empresarial de la economía social

un sesenta y cinco coma dos por ciento de la facturación se asocia a la exportación cinco coma cinco puntos porcentuales por encima del cincuenta y nueve coma siete por ciento

el mayor avance desde el año dos mil cuatro y en lo que respecta al empleo destaca la mayor capacidad de generación relativa de empleo por unidad de producto

por eso creemos los socialistas que con la modificación legal en los términos que seamos capaces de acordar y consensuar

un nuevo ejercicio de puesta en valor positiva de la contribución del cooperativismo vasco de la economía social al tejido productivo y socio económico de euskadi nada más y muchas gracias

egun on guztioi la posición del grupo elkarrekin podemos es favorable a la iniciativa presentada por el grupo popular

comenzar la explicación de voto haciendo referencia a la influencia que ha tenido la crisis en el desarrollo de la economía social

y de los valores arraigados durante una época pero en su cara positiva las crisis facilitan la catarsis la ruptura con las estructuras obsoletas la aparición de nuevos horizontes y el tránsito hacia otros valores

eta edonoren gainetik norberaren igoera besteen lepo en esta catarsis que ha supuesto la crisis económica

hacia otras realidades hacia otras formas de vivir de consumir y de trabajar

del enriquecimiento infinito como forma de vida y del éxito individual por encima de cualquier otra consideración y así hemos descubierto que aquí

pero igualmente capaces de generar riqueza y empleo iniciativas capaces de anteponer las personas y el fin social colectivo por encima de los resultados económicos

más democrática y participativa hoy en día cada vez existen más empresas que forman parte de lo que se ha denominado la economía social llámense cooperativas

o asociaciones sin ánimo de lucro en la actualidad la economía social se encuentra cada vez más presenta en muy diversos ámbitos que conforman de manera directa el tejido productivo de euskadi

tan solo por eso ya merece la pena apoyar esta proposición de ley que hoy presenta el grupo popular que a nuestro juicio incluso se queda corta al proponer la entrada de una única representante de la economía social en el consejo de administración de la spri de hecho consideramos que la dispar realidad de la economía social demanda hoy una presenta más completa y plural

relacionadas con la economía productiva el desarrollo económico o las relaciones laborales azken finean gizarte ekonomia solidarioari

porque de cara al futuro nuestra sociedad necesita un nuevo modelo de empresas

que hagan posible aprovechar el desarrollo humano de sus integrantes que regulen la participación de las personas trabajadoras tanto en la gestión y en el capital como en la distribución de los resultados necesitamos un modelo humanista de empresa que conjugue la creación de empleo y de riqueza con el desarrollo local

la cohesión social la inserción de personas en riesgo de exclusión social

en definitiva para elkarrekin podemos la economía social no es un simple agente económico más

reside en el papel que cada grupo creemos que debe jugar la economía social porque aún siendo muy importante su potencial para la creación y el fomento del empleo las empresas de la economía social y solidaria son hoy en día un claro ejemplo de cómo

son compatibles de cómo la eficiencia empresarial puede convivir con la responsabilidad social

y sociales de cómo en definitiva otra forma de hacer empresa es posible mila esker eskerrik asko becerra jauna

ondo zegoela gizarte ekonomiaren berezitasunak goraipatzea eta gehitu nuen la economía social no es algo anecdótico es un agente activo y como tal debe ser tratado en todos los ámbitos ba hona hemen esparru bat gizarte ekonomiaren paper aktiboa

aitortzeko para euskal herria bildu no hay duda de que la economía social es fundamental en nuestra sociedad en el desarrollo de nuestro país y como tal

diciéndole lo interesante que es su apuesta por el empleo o por las personas o lo mucho que se valoran sus principios de gestión empresarial no puede ser que nos mostremos tan orgullosos de la fuerza e implantación de la economía social en nuestro país y a la vez el gobierno se permita clasificarlo como

asociacionista en un intento de minimizar su entidad tratémoslo como lo que son agentes activos de la economía vasca en el ámbito de trabajo de la spri hay muchas empresas de economía social cooperativas que llevan años desarrollando su labor en el sector acaso no es interesante su punto de vista su experiencia para cumplir los objetivos de la spri no sería interesante el punto de vista de estas empresas

la defensa y la creación de puestos de trabajo dentro del proceso de lucha contra el paro que es según la ley cinco barra mil novecientos ochenta y uno objetivo prioritario

unos datos quince centros propios de investigación veinte proyectos de colaboración europea

en ventas tendrían ustedes en cuenta la opinión y experiencia

a la hora de por ejemplo diseñar políticas para el fomento de proyectos de investigación y desarrollo o para fomentar las actuaciones comunes y de cooperación entre empresas

de un grupo empresarial de un grupo cooperativo que hoy por hoy no puede aportar nada directamente

porque en su consejo de administración no hay nadie que lo represente

sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi la verdad es que por las circunstancias voy a explicar un voto que aún no hemos emitido

pretenden favorecer el desarrollo y competitividad del tejido empresarial

mientras que las políticas activas de promoción de la economía social corresponden más al ámbito del departamento de trabajo y justicia más concretamente

aunque confebask que forma parte del consejo de administración de spri aglutina el mayor número de empresas de euskadi que constituyen el público objetivo de los instrumentos de política

a los agentes externos en el consejo de administración de spri está suficientemente garantizada con la presencia de confebask conjuntamente con cámaras de comercio y con elkargi

debe ser lo más práctico y operativo posible lo que presupone que se ha de contener su dimensión a lo estrictamente posible y representativo

pudiera generar demanda lógica en el mismo sentido de otros colectivos asociacionistas de carácter sectorial o territorial

incluso aunque desde mil novecientos ochenta y uno ha venido funcionando la sociedad spri con normalidad

la ley su constitución y sin haber mostrado nadie de este parlamento y todos los grupos de este parlamento exceptuando podemos han formado parte del gobierno o han apoyado al gobierno en algún momento en estos treinta y seis años

sino la curiosidad de añadir ningún representante empresarial o asociativo a su consejo de administración

sino como ya he dicho exitoso y aunque todavía no lo han podido ver ni comprobar vamos a votar que sí a esta proposición de ley no se trata de no valorar la economía social como un valor fundamental del desarrollo económico de euskadi no se trata de no reconocer

por su apuesta por la creación de puestos de trabajo y de riqueza para euskadi se trata de que si una sociedad pública como spri lleva treinta y seis años operando de un modo muy exitoso por cierto

sobre sus modificaciones en su consejo o en su manera de ser se trata de que si tampoco la economía social ha sufrido cambios sustanciales durante estos treinta y seis años de existencia de spri y tampoco ha reclamado una especial atención para ocupar un asiento en el consejo de administración de spri pues la verdad

a una modificación que nadie ni siquiera había sugerido en treinta y seis años y que al hilo del funcionamiento normalizado de la propia spri tampoco se había siquiera pensado

ante la solicitud del grupo popular y escuchada a parte de la economía social en concreto la confederación de cooperativas de euskadi que mostró su acuerdo en participar en tal consejo

en definitiva y aunque llegue treinta y seis años después de no haberse cuestionado un funcionamiento normalizado de su organización y óptimo en resultados nosotros

pues el refrán de que nunca es tarde si la dicha es buena y en cualquier caso nos vemos en la ponencia eskerrik asko tellería jauna

traíamos nuestra proposición de ley sobre ingresos adicionales para la hacienda general del país vasco son ya semanas las que venimos hablando sobre esa propuesta tanto con el consejero

o difundiéndolo a la ciudadanía nuestras políticas en materia fiscal para nuestro grupo parlamentario es imprescindible hablar del sistema fiscal

de la solidaridad y de la justicia social sin embargo como decía hay otros que prefieren pasar de puntillas ante el tan temido fantasma de la reforma fiscal

de un suelo de ingresos adecuado se solucionara por sí mismo y mientras a veces se emulan a los niños y a las niñas que con ese punto de inocencia

ustedes dejaron hace tiempo de ser niños y niñas

esta cámara el proyecto de ley de presupuestos el señor azpiazu ya se había apresurado en dejar claras dos cuestiones en prensa la primera nos presentó

como se pinta y que el gobierno vasco mantiene una injusta gestión de la crisis hoy en día rebautizada como insuficiencia de ingresos

y así han ido pasando las semanas entre aterradoras alianzas neoliberales insuficiencias de ingresos

siempre sin holguras estamos de acuerdo en la descripción del problema de insuficiencia de ingresos del gobierno

intencionada ese debate ese diagnóstico no se concrete en medidas que le den solución creemos que es el momento de ponerle el cascabel al gato de la reforma fiscal desde elkarrekin podemos hecho mediante esta proposición de ley en este mismo parlamento ya es momento de dejar atrás meses de mucho ruido y de pocas nueces es hora de que dejen de marear la perdiz de los ingresos y de que debatamos sobre soluciones concretas inmediatas y factibles por ello

una solución concreta una solución que consiste en una subida de algunos impuestos mediante recargos para gravar a especuladores inmobiliarios a rentistas a las grandes herencias a los beneficios de los grandes empresarios y el juego una solución que empezaría a generar ingresos para el gobierno vasco ya en este año dos mil diecisiete es además una solución factible porque la propia ley reconoce al parlamento vasco esta potestad al margen de lo que digan las diputaciones

a los discursos grandilocuentes y a los juegos florales en esas negociaciones pasadas de presupuestos creemos que por responsabilidad

los partidos políticos tenemos la obligación de poner soluciones encima de la mesa es urgente hacerlo ya y por ello no veíamos conveniente esperar más para dar una solución al problema la ley de principios reguladores de la hacienda general del país vasco que data de mil novecientos ochenta y tres y modificada en los años ochenta y ocho noventa y siete y dos mil quince confiere al parlamento vasco la competencia de establecer recargos entre otros en impuestos como el irpf

sucesiones y donaciones por citar algunos ejemplos de hecho el artículo treinta y cinco de esta ley

podrá establecer recargos en estos impuestos a través de leyes a tal efecto y en relación a ese artículo que dota de competencia para ello al parlamento vasco ni más ni menos

no defendemos hoy una medida sin precedentes no se confundan el artículo treinta y cinco ya se usó en el año ochenta y tres por el entonces lehendakari carlos garaikoetxea para sufragar los gastos extraordinarios de las inundaciones de aquel año mucho más recientemente en el año dos mil doce fue el lehendakari socialista

la recaudación pero más aún en el año dos mil catorce

hoy alcalde de bilbao pero en ese momento consejero del gobierno vasco proponía

se trata por lo tanto de una fórmula legal que se ha empleado ya en una ocasión y que se ha barajado en varias ocasiones por gobiernos tanto

como de partido socialista de euskadi consideramos adecuada la introducción de esa proposición de ley para poder realizar unos impuestos más expansivos y justos que dieran una mejor respuesta a la ciudadanía

a la ciudadanía a las personas en el centro mediante unas políticas basadas en la justicia social establecer la justicia social como principio para el gasto pero también como principio indispensable en los ingresos

no minorarían los ingresos de los territorios históricos y precisamente permitirían incrementar los recursos de los presupuestos generales de la comunidad

en un momento en el que a tenor de las declaraciones del señor consejero de economía y hacienda en su comparecencia en la comisión incidía expresamente en la necesidad de recaudar más en un tiempo particularmente ajustado y sin holguras así mismo

ha señalado esa insuficiencia de ingresos como causa para no poder atender a necesidades sociales o a la mejora de los servicios públicos sin embargo nos encontramos frente a un criterio del gobierno

que sinceramente no logramos entenderlo del todo bien en los puntos uno y dos del mismo argumentan que la política fiscal

progresivo solidario suficiente y eficiente que garantice un óptimo equilibrio entre los ingresos y gastos públicos pero que permita una redistribución de las cargas entre las y los contribuyentes además esta debe estar al servicio del crecimiento económico la creación de empleo

nosotros sí creemos que la política fiscal debe ser un instrumento para el desarrollo económico y la generación de empleo de calidad

desde dos perspectivas por un lado con una acción redistributiva para transportar recursos desde quienes más tienen y los acumulan

para poder dirigirlos a los objetivos de potenciar la actividad económica el empleo o los sistemas de bienestar y protección social por otro lado

en potenciar el desarrollo económico por medio de los salarios pensiones y prestaciones que sostienen el consumo por ejemplo gastar en creación

o en educación es sinónimo de ampliar la base salarial de la economía vasca que generará actividad y más empleo que con una reforma fiscal como lo que se está planteando se haría detrayendo recursos de quienes atesoran acumulan

que no generan ningún tipo de utilidad social no obstante

y los recortes en el sur de europa han tenido un efecto desmultiplicador en la sociedad

últimos duros años perjudicando y agravando la situación de las clases

veían como sus fortunas eran multiplicadas por lo tanto quien se opone a incrementar impuestos para poderlos orientar a un gasto que precisamente permite generar crecimiento en realidad no está defendiendo los intereses de la mayoría de la sociedad vasca

de una minoría acomodada y pudiente el mantra de la competitividad empresarial

habitualmente articulados para defender los intereses concretos de las élites económicas y financieras

los costes y precios no son los únicos factores de competitividad ni muchas veces los principales de la misma forma que los costes fiscales

tampoco suponen la parte principal de sus costes y no determina su competitividad podemos observar como solo cuatro países de europa

y no son precisamente ni los más competitivos ni los que mayor crecimiento tienen ni los que empleo de mayor calidad crean son exactamente grecia

que nosotros perseguimos yo creo que no creo que debemos mirar más allá y converger con las locomotoras de europa y no

el punto tres del criterio del gobierno argumenta entre otras cosas que euskadi requiere un sistema tributario armonizado que garantice una presión global equivalente

claro uno de los pilares del neoliberalismo sistemas fiscales regresivos donde imperen los impuestos indirectos

nuestro grupo parlamentario cree que la presión fiscal no debe ser equivalente en toda la ciudadanía vasca y que los más pudientes deben tener una mayor presión fiscal

ahí sí creemos que debe estar coordinada y armonizada por eso proponemos precisamente que los recargos se apliquen en los tres territorios ni más ni menos en el punto cuarto del mismo criterio del gobierno se argumenta que cualquier

que entro en vigor si mal no recuerdo en dos mil catorce a falta de conocer informes o estudios específicos que recojan correctamente los efectos de una reforma fiscal de forma independiente

creemos que la mejor evaluación de la política fiscal es analizar la evolución de los datos de recaudación

el gobierno tiene oportunidad en las reuniones del consejo vasco de finanzas de realizar una evaluación de los motivos

no se realiza a priori ninguna valoración sobre los motivos de las desviaciones y la menor recaudación tampoco de aspectos tangenciales como la elusión fiscal

o las acciones realizadas en el ejercicio dos mil dieciséis para reducir el fraude fiscal y su impacto

análisis y valoración que debieran ir unidos sistemáticamente al análisis de la evolución recaudatoria de todos modos la reforma fiscal lleva ya en vigor tres años en los que creemos que ha habido

para su evaluación el punto cinco del criterio argumenta que en euskadi solo se ha utilizado una vez esta posibilidad de recargo fue en la circunstancia transitoria y muy excepcional

condiciones extraordinarias que ahora no se producen esto es mentira

ya que el recargo sobre la tasa de juego está en vigor desde hace trece años y sigue en vigor el punto seis del criterio del gobierno

a impuestos forales es contradictorio con nuestro modelo

en la sesión plenaria de veintidós de junio de mil novecientos ochenta y tres

el proyecto de ley de principios ordenadores de la hacienda general del país vasco dijo y cito textualmente para no tergiversar sus palabras en nuestro país el propio estatuto a diferencia de otras comunidades autónomas reconoce a las instituciones competentes de los territorios históricos

de carácter tributario en base al concierto económico lo cual introducía en este punto un aspecto de singular dificultad para definir competencias por un lado de este parlamento que no interfieran en las que obviamente corresponden al estado en algunos aspectos de ordenamiento y por otro lado las que corresponden a los territorios históricos en materias de su competencia en base al concierto económico y decía creo que la regulación está bien pensada

tributaria es uno de los logros de esta ley sinceramente a raíz de esas palabras

entiendo yo que los recargos según el propio consejero de hacienda y economía es uno de los logros de la ley de principios ordenadores de la hacienda general del país vasco un logro de la potestad tributaria un logro que ha sido esquinado durante décadas y del que hoy en día se reniega

autonomía y suficiencia financiera precisamente lo que usted señor azpiazu dice que le falta por eso no entendemos por qué el gobierno vasco hoy en día argumenta que el establecer recargos

por lo tanto y voy finalizando desde nuestro grupo parlamentario ponemos sobre la mesa una alternativa factible legal muy concreta que ya se ha llevado a cabo en alguna ocasión y que podría reportar en total doscientos quince de euros de ingresos adicionales sin embargo lo planteamos de manera que los efectos recaudatorios no serían inmediatos este año dos mil diecisiete

sobre compraventas de inmuebles que no sean vivienda habitual y sobre el juego entre estos tres se alcanzaría una cifra cercana a los ciento quince millónes de euros por ejemplo para hacernos una idea de lo que esta cifra supone

a la subida del salario mínimo interprofesional tiene un impacto de treinta y cinco millónes de euros una medida que la ciudadanía viene reclamándola como necesaria y desde aquí no me gustaría dejar pasar la oportunidad para mandar todo el apoyo

que llevan ya catorce días en huelga de hambre luchando por los derechos de todos y de todas badakizue zuekin gaudela eta denon elkartasuna medio

de otros cien millónes de euros adicionales en dos mil dieciocho para entender la magnitud de esa cifra de doscientos quince millónes de euros se podría comparar con el incremento que ha previsto el gobierno para este año que es de ciento veintiséis millónes de euros y lo ha hecho hipotecando a toda la ciudadanía vasca a través del aumento del endeudamiento bruto

una fuente muy relevante de ingresos propios extra

inmediatos el objetivo es poder sostener la inversión social y la creación de empleo que necesita euskadi y hacer que esa inversión la paguen las personas que más tienen cargando a los beneficios de las grandes empresas

porque nosotras y nosotros ni queremos ni entendemos un país que trate de manera injusta a su ciudadanía más vulnerable por justicia social
progresivicemos la regresividad actual eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna

muchas gracias señora presidenta señor bollaín yo tengo que reconocerles

de traer esta proposición de ley que nos han traído

o digamos listillos con el permiso de la mesa que le ha dado pase a algo

ustedes como querían subir los impuestos y hoy nos lo ha dicho aquí reiteradamente y como sabe que en este parlamento no tenemos competencia para ello

los recargos en cualquier impuesto multas son sobre la cuota

son sobre la cuota a pagar no se recargan los tipos

subo los tipos de los impuestos eso es hacerse trampa en el solitario y usted lo sabe y nosotros lo sabemos

usted ha venido aquí con una proposición de ley diciendo con esto podemos recaudar más cuando usted sabe que se está haciendo trampas en el solitario que esto no se puede hacer

a subir los tipos de los impuestos y solo por este motivo

a esas competencias que usted citaba de aquel consejero cuando decía cuáles eran las competencias de unos y de otros incluso la disposición adicional de la constitución que ampara los derechos históricos de los territorios forales

verdad votaríamos en contra y punto pero quiero recordarle pero yo sí voy a entrar en lo que usted propone

que queda muy bien y que es muy bonita pero luego plantean siempre la contraria usted habla de insuficiencia de ingresos

o excesivos gastos pues no han presentado ustedes enmienda reduciendo gastos en varios departamentos

nos dice otros consejeros y otros gobiernos se plantearon en su día

pero que luego nunca han venido a la cámara esta ocurrencia suya sí es la primera vez que viene y declaraciones de ocurrencias de consejeros tenemos varias de varios partidos y de varios grupos ahora ustedes qué nos proponen de verdad nos dice para recaudar más impuestos planteamos esto y entonces nos dice queremos que las grandes empresas paguen más eso es lo que usted nos ha dicho

del gravamen de las normativas forales del impuesto de sociedades es decir de todas las empresas y yo aquí le tengo que recordar porque usted sí que sabe que esas grandes empresas que usted dice cotizan con la normativa estatal

aquí las que sí están sujetas al tipo del impuesto de sociedades que por cierto tenemos el más alto de toda españa son las microempresas las pequeñas y las medianas empresas a estas microempresas pequeñas y medianas

el dos por ciento adicional del tipo general que ya tenemos el más alto de españa no a las grandes por eso le digo que aquí viene haciendo discurso pero luego la realidad de lo que plantean

luego nos dice vamos estamos en contra de los rentistas

en el artículo dos recargo sobre la base del ahorro incremento del veinte por ciento de todos

el mundo rentistas y no rentistas graban el ahorro da igual si es mucho poco o nada porque

y yo no veo su progresividad en ninguna de las propuestas ni siquiera en esta y yo le tengo que decir que además nosotros

nosotros creemos que hay que incentivar el ahorro que ahorrar es bueno es bueno lo contrario que ustedes que

que hay por europa y que dice que los países del sur nos gastamos el dinero en lo que sea pues no sé si su propuesta es no hay que ahorrar y hay que gastárselo en lo que sea

para todos los ciudadanos pero volviendo a las empresas porque ustedes también son de los que dicen es que el impuesto de sociedades se recauda menos oiga hace poco el otro día sin ir más lejos salieron los datos del saldo de empresas de país vasco que se han ido a otras comunidades autónomas más de sesenta

básicamente se han ido a madrid claro recaudamos menos ese es el saldo en número de empresas pero el saldo de las empresas del país vasco que se han ido que facturaban más de trescientos cincuenta millónes de euros lo compensamos con empresas que han venido al país vasco que no facturan quince millónes de euros usted por qué cree que algunas empresas vascas han preferido irse a madrid porque pagan más o porque pagan menos esas empresas crean empleo aquí

pagan ahora impuestos aquí o pagan allí y usted propone vamos a subirles a esas pymes vamos a subirles un poco más el impuesto de sociedades porque esto de la competitividad es una fábula que nos hemos inventado algunos

ese es su discurso y lo que nos ha dicho hoy aquí sucesiones y donaciones vamos a subir el seis por ciento adicional a las herencias de padres a hijos al resto no

será que son los más ricos del lugar entonces vamos a subir el tipo a y además da igual cuál sea la escala o cuál sea ya le digo su progresividad brilla por su ausencia

distintos de la vivienda habitual y supongo

en la ley de principios ordenadores el impuesto de actos jurídicos documentados pero al parecer no saben que son distintos

lo han mezclado total que suben el tipo del dos por ciento a todos los actos jurídicos documentados

da igual si es para vivienda si no es para vivienda da igual cualquier escritura sea la que sea sea la que sea

la compra de la segunda vivienda deben ser los superespeculadores los que aspiran a poder comprarse una segunda vivienda pero no se preocupe si ya se carga usted el ahorro al principio

que pueda especular de esa forma aunque para especuladores de viviendas sociales ya conocemos en su grupo algún fenómeno que es capaz de ingresar

en seis meses sin pagar la vivienda pero bueno y luego el último el último que es el recargo

me ha sorprendido de la cuota líquida a pagar y yo le voy

de hacienda socialista el que trajo a esta cámara una propuesta para bajar el tipo que tenemos competencia

casualmente aquí tenemos competencia para bajar el tipo o para subir al tipo el tipo

la actividad del juego y cuando nosotros le preguntamos a qué se debía porque hombre nosotros no es precisamente un impuesto que entendamos que hay que bajar sino quizás todo lo contrario pero bueno es decir

nos dijo que es que el sector iba tan mal se estaba recaudando tan poco que había que bajar el tipo

más ingresos y este consejero de hacienda era del partido socialista oiga y nosotros

porque a lo mejor resulta que bajando los tipos se recaudaba más

y por lo tanto cuando yo le digo que ustedes dicen unas cosas y plantean las contrarias

el consejero de hacienda socialista que había que hacer para recaudar más

usted hace lo contrario por lo tanto yo le repito

salir aquí a hablar del discurso de defender a todo el mundo

pero en su propuesta eso no viene aquí ustedes van contra todo el mundo

no minorará los ingresos de los territorios históricos oiga porque usted lo diga porque si se van más empresas que pagan impuesto de sociedades

disminuyen los ingresos de los territorios históricos si usted grava el ahorro aquí pues los ahorradores ahorrarán en otro sitio o se irán a otro sitio a ahorrar

y eso afectará a los ayuntamientos y a las diputaciones claro que afecta

el modelo de podemos hasta donde yo recuerdo desde su nacimiento con el señor tsipras al frente es el griego

al resto de los países europeos ese y el venezolano que son sus dos referentes claro son los referentes políticos fuera de aquí que ustedes tienen que ustedes han avalado y que ustedes han defendido ahora no me venga diciendo que su modelo no es el griego claro que su modelo es el griego y lo han defendido nosotros estaremos encantados

se centren un poco y presenten propuestas en materia de fiscalidad que la buena intención de vamos a recaudar más se puede traducir en recaudar menos y a lo mejor se centran en que la fiscalidad además de recaudar para que las administraciones

sirva para mejorar la economía y la calidad de vida de la gente y que se pueda crear empleo

y cuantos más beneficios tengan más pagan porque sí tenemos progresividad en el sistema fiscal que tenemos

se recaudará más que es lo que ha ocurrido siempre y la fiscalidad tiene que ir encaminada a eso a favorecer el crecimiento de la sociedad y el crecimiento de las empresas y que se creen más empleos y de más

por la forma y por el fondo nosotros votaremos en contra eskerrik asko damborenea jauna

de mencionar cuba señor damborenea bueno me ha comentado usted

que hay que dejar claro yo creo que también que el impuesto de sociedades es sobre los beneficios

como afirma el último informe de ela principalmente subir un dos por ciento

importantes sino en las microempresas como usted ha recalcado gastos fiscales que para el impuesto de sociedades en dos mil diecisiete

las empresas no se van por más impuestos señor damborenea igual que no afecta a la competitividad

que la propuesta del partido popular en este caso es que las empresas no paguen pues bueno esa es vuestra propuesta y ese es el sentido

están llevando y que como usted bien dice los liberales defendéis pero las empresas no se van por más impuestos tenemos casos claros

un cuarenta y seis coma ocho por ciento de presión tenemos casos como finlandia un treinta coma cinco por ciento

un treinta y ocho coma tres por ciento euskadi presión fiscal veinte coma seis tenemos otro caso como islandia del treinta y tres coma ocho por ciento allí salieron de la crisis encarcelando a sus banqueros aquí sin embargo gracias a ustedes y con el dinero de todos rescatamos a los bancos como bankia con más de veintidós mil millónes de euros y el tema de los impuestos

recalcar una vez más patxi lópez en el gobierno socialista decía que el gobierno vasco

que en determinadas circunstancias el parlamento vasco puede aprobar recargos en algunos impuestos entre ellos el irpf y el lehendakari

que su gabinete estaba estudiando las posibilidades que tiene

intervenir en los ingresos no solo en gastos de las administraciones públicas vía recargos el mismo juan maría aburto decía

reforma fiscal que genere más recursos para el sistema de protección social

propuso un recargo impositivo para atender a la dependencia más recientemente el señor consejero azpiazu

cito textualmente todos los instrumentos que tenemos en nuestras manos en materia de fiscalidad para lograr incrementar la recaudación y que teniendo en cuenta

usa usted un juego de palabra que la presión fiscal en euskadi no es mayor que en españa y es menor que en europa

para hacer algo y sin duda la vía para hacer algo inmediata factible y legal es

sí sabía de irán pero vamos como dechado de virtudes y de libertades individuales y colectivas

para que la gente viva fantásticamente especialmente los autóctonos

toda la recaudación de todos los impuestos no solo sobre el impuesto de sociedades y usted me dice

que no me diga una cosa aquí y luego me planteé la contraria su propuesta es subir el tipo del impuesto de sociedades a las pymes vascas que por cierto

y son las que pagan conforme a la normativa foral sí porque las grandes aunque paguen aquí pagan conforma a la normativa del estado y si no léanse el concierto económico

y eso que usted dice de las grandes empresas se lo dije ya hace un mes

plantea allí en el congreso de los diputados que es el que lo planteó no ustedes lo planteó el señor montoro pero apóyenle

ahora y me dice que

que en irlanda en los últimos diez años

incluidas algunas españolas o catalanas si usted prefiere muy independentistas pero que trasladaron el domicilio de barcelona a dublín

usted por qué cree que han hecho eso por qué en irlanda se vive mejor van a vender más

van a facturar más o lo han hecho por un tema de impuestos

yo le hago la pregunta porque claro si no es por los impuestos yo supongo que usted tiene algún otro motivo

y entonces han decidido todos irse allí desde las tecnológicas hasta casi todas

en la city de londres bajaron el impuesto de sociedades hace dos años lo hicieron para recaudar menos o para recaudar más

y ahora recaudan más oiga las cosas que funcionan por qué no se plantean ustedes copiarlas ya sé que gran bretaña no es un modelo ni irlanda ya sabemos cuál es modelo cuba me acaba de decir que es su modelo me parece muy bien

de referencia que tienen ustedes nosotros queremos que la gente viva mejor nosotros queremos

y que todo el mundo gane más dinero y se lo dije el otro día y es evidente

no tiene nada que ver con las cosas que ustedes plantean pero es que su discurso con sus propuestas son contradictorias usted no ha venido aquí no nos ha traído una propuesta para gravar a las grandes empresas

para que las pymes vascas paguen todavía que ya son las que más pagan de españa paguen más esa es su propuesta léaselo artículo primero

se sube el tipo a todas esa es su propuesta no hay ninguna excepción y de las rentas del ahorro

pero le repito por la forma primero porque no tenemos competencia para este lio que ustedes han querido montar aquí

también como lo sé yo esto es intentar subir los tipos haciendo trampa y se lo he dicho desde el principio y evidentemente nosotros sí estamos a favor del concierto económico sí estamos a favor del estatuto y sí estamos a favor de la constitución y por lo tanto le repito que votaremos en contra

egun on guztioi bueno el grupo socialista votará en contra de la toma en consideración de la propuesta que ha realizado elkarrekin podemos

para aumentar los ingresos estableciendo recargos de forma indiscriminada en determinados impuestos porque es una propuesta traída a última hora con poca seriedad

motivada únicamente por la urgencia de su propio grupo proponente para construirse un discurso que justificara su voto en contra a los presupuestos

contradictoria e incongruente se me ha explicado algún ejemplo un especulador inmobiliario para podemos es aquel que compra un local

un especulador inmobiliario es aquella persona que habiendo sufrido un ere en su empresa tiene que alquilar su vivienda para poder pagar

todos estos ejemplos son del recargo que nos propone podemos se lo dijo mi compañera susana corcuera en el debate de enmiendas a la totalidad y probablemente yo lo repita el próximo martes

todos todos hemos podido hacer propuestas desde el inicio y yo creo que alguien ha dejado los deberes para tarde porque si uno pretende cambiar la política

algo que los socialistas estamos haciendo y que ha dado lugar a un acuerdo para cogobernar euskadi durante una legislatura y que ya incluía

hablando de los ingresos o de su revisión

hablando de ello tanto así que hace tres años se hizo una reforma fiscal otros en cambio los proponentes no han tenido tanta prisa su única urgencia estaba en pedir que esto que hoy vamos a rechazar lo hiciéramos de forma urgente que lo rechazáramos

y hubo prisas porque como han dicho algunos otros

y se acordaron de los ingresos cuando se registraron los presupuestos y porque tenían que construir una justificación a ese no rotundo que les querían dar

no es seria y precisamente en este tipo de actuaciones en las que hablamos de modificar el sistema tributario de nuestro país no podemos trabajar de esta forma no podemos traer

nuestra posición y cuál es nuestra idea para modificar el sistema

materia fiscal y son dos cuestiones la primera una convicción que usted me la ha leído porque viene también en el criterio del gobierno y la segunda es un procedimiento las convicciones que tenemos los socialistas de que la fiscalidad es una herramienta

y que debe tener un objetivo fundamental que es configurar un sistema equitativo progresivo solidario suficiente y eficiente

equilibrio entre los ingresos y los gastos y que tiene que contribuir a generar riqueza

y desde luego a ello responde la reforma fiscal que se hizo en el año dos mil trece y a ello debe de responder cualquier modificación del sistema tributario que se realice a esto

y que son conocidos de conocimiento público porque ya se pusieron negro sobre blanco cuando firmamos el acuerdo para la reforma fiscal

en el acuerdo de gobernabilidad y es que había que tener un proceso de evaluación transcurridos tres años desde que se pondría en marcha la reforma fiscal resultados cumplimiento de objetivos virtudes y defectos y precisamente en ello y lo conocen ustedes están trabajando en este momento las cuatro administraciones vascas

ni necesidad de armar argumentos sino con seriedad y con la minuciosidad que este tema requiere y en breve ténganlo por seguro vamos a conocer

propondremos las modificaciones necesarias pero desde la realidad de saber a quién afecta cada medida y sin generalidades ni urgencias y eso es lo que vamos a hacer

nosotros no tenemos miedo a comprometernos en la solución de los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas ya veremos qué hacen otros cuando llegue el tiempo eskerrik asko

noizbait honetaz hitz egin beharko dugu legebiltzar honetan para euskal herria bildu la necesidad de una reforma fiscal es una realidad perentoria no solo porque hay un problema más que evidente de recursos públicos para financiar políticas públicas en beneficio de las personas del impulso de nuestra economía y del desarrollo de nuestra sociedad

no cumple con sus objetivos no sirve para recaudar lo esperado no consigue que la redistribución de la riqueza sea efectiva y lo peor de todo no es justo ni equitativo

mientras de los beneficios empresariales o de la riqueza improductiva cada día se recauda menos así y todo

porque el problema de la política fiscal de este país es mucho más profundo no es que no se ha recaudado un año lo esperado por una situación puntual de la economía no no es así es que los impuestos en vigor están diseñados de tal manera que aun en un entorno donde las grandes empresas del país anuncian a bombo y platillo

no pagan apenas impuestos ya lo dijimos en esta cámara y lo volvemos a repetir con las herramientas que existen cumpliendo ese círculo virtuoso de instituciones comunes instituciones de territorios históricos y órgano de coordinación tributaria se puede y se debe abordar una reforma fiscal desde el debate público porque la política fiscal no es algo reservado a los entendidos porque la política fiscal nos afecta a todos y a todas y por ello creemos imprescindible articular mecanismos que faciliten

luego ya realizará las modificaciones pertinentes el órgano o administración que le corresponda

una vez más que la política fiscal de nuestro país la decidan cuatro en un despacho a espaldas de la ciudadanía

tribunal vasco de cuentas públicas herri kontuen euskal epaitegiaren otsailaren bosteko

bueno el pasado mes de enero elkarrekin podemos presentaba su propuesta de prioridades en el parlamento vasco

fiscalizadora del tribunal vasco de cuentas y en esta lista se presentaba el parlamento vasco como objeto fiscalización para los ejercicios dos mil doce a bi mila hamabost dicha propuesta no se nos admitió a trámite alegando

excluyendo cualquier tipo de control externo sobre el presupuesto parlamentario cuestión que elkarrekin podemos no cuestiona se menciona el artículo dos de la ley uno barra mil novecientos ochenta y ocho del cinco de febrero del tribunal vasco de cuentas públicas que regula el ámbito y extensión del control financiero

somos partidarios de aplicar el espíritu de la ley de transparencia más allá del portal de transparencia de la página web de esta cámara y del tribunal vasco de cuentas públicas

que el fiscalizador sea fiscalizado creemos que es una oportunidad para incrementar el nivel de transparencia de este parlamento como elemento de buena gobernanza

por todo lo anterior elkarrekin podemos presenta esta proposición de ley para modificar la ley uno barra mil novecientos ochenta y ocho de cinco de febrero del tribunal vasco de cuentas públicas

incluyendo además criterios de igualdad de género sostenibilidad ambiental o transparencia tal y como explicamos en la exposición de motivos de la proposición de ley los dos primeros artículos tratan de responder a la necesidad de integridad institucional

que de él dependen para lo cual habrá que dotarse de los mecanismos adecuados para la fiscalización de las cuentas del propio tribunal vasco de cuentas públicas el tercer artículo hace referencia a las materias objeto de la actuación del tribunal vasco hasta

en verificar si las cuentas se realizaban de acuerdo con las normas contables y el ordenamiento jurídico vigente sin prestar atención si la gestión era eficaz

se hacen necesarias nuevas medidas para cambiar el rumbo hacia las auditorias operativas incorporando aspectos como la eficiencia entendida como la capacidad

utilizando un mínimo de recursos de igual forma incorporar parámetros

en definitiva se trata de dotarnos de instrumentos que permitan evaluar los sistemas de compra o contratación y fiscalizar ingresos

no responden a la finalidad de la institución y en consecuencia ampliar la materia objeto de fiscalización también hacia un control de oportunidad por último

reiterada por parte de los tribunales de cuentas autonómicos de una mayor colaboración y cooperación con sus parlamentos se trata

el propio tribunal pueda emitir un informe preceptivo la actual crisis político institucional nos obliga a hacer frente

y esto pasa por abrir las ventanas de las instituciones y construir una administración responsable para con su ciudadanía

gracias señora presidenta eguerdi on guztioi señor consejero señorías muy brevemente para explicar el sentido de voto del grupo parlamentario popular en torno a esta proposición de ley y para

nos parece razonable y nos parece interesante el debate que se plantea por parte de podemos y sin adelantar

tengamos oportunidad de debatir sobre la materia decirles que votaremos a favor

que en esta cámara avancemos a la hora de ganar en transparencia y ser exigentes también con los órganos de control de los que nos hemos dotado

no solo este parlamento sino instituciones públicas a las cuales también nos debemos por lo tanto nuestro sentido de voto será a favor y participaremos en el debate de la proposición de ley con mucho interés pero quiero también compartir con ustedes en segundo lugar un dato que no debe de pasar desapercibido

ya está en tramitación también una proposición de ley impulsada por partido popular que también pretende cambiar algunos aspectos

del contenido del tribunal vasco de cuentas una proposición de ley que presentamos esta legislatura pero que también fue presentada la pasada que la pasada legislatura y les quiero recordar que es una proposición de ley que consta de dos artículos

la pasada legislatura sufrió yo creo que está bien expresado cómo sufrió dos peticiones de ampliación de plazo

dos por parte del grupo parlamentario socialista y una por parte del partido nacionalista vasco terminó la legislatura hemos iniciado una nueva

y hemos vuelto a tener dos peticiones de ampliación de plazo de quince días cada uno una

de los nacionalistas vascos no parece razonable que un debate o que una proposición de ley mejor dicho de dos artículos que ya tuvimos oportunidad de conocer

que se vuelve a presenta esta y que vuelve a recibir dos ampliaciones de plazo alguien podría sospechar que lo que se intenta es a través de una maniobra parlamentaria legítima

la oportunidad de que esta cámara pueda debatir sobre esta materia yo solo confío

desde luego lo que sí también le puedo adelantar es que el grupo parlamentario popular no va a presentar ampliación de plazo

y esperemos que de una vez por todas podamos tener estos debates con profundidad

salgo a tribuna aunque pensaba hacerlo del escaño porque he tenido ciertas dudas de si lo que decíamos era justificar el voto o estábamos en un turno

no voy a entrar más que en decir que cuando se propone el debate de una ley ese debate tiene que ser sereno y que no tiene que molestar que los parlamentarios tengamos que tener el tiempo suficiente para realizar las propuestas con sensatez y con razonabilidad y poder contrastar determinados

lo que sí es cierto es que no hay riesgo de que se acabe la legislatura y que por tanto haya ninguna maniobra dilatoria detrás de ninguna solicitud de ampliación del plazo

y que se utilizan en caso de ser necesarias yo empezaba mi intervención el pasado diecisiete de enero diciendo que los socialistas decía entonces hoy como hace año y medio consideramos oportuno abordar la reforma no solo de esta ley sino de las que afectan a los organismos que dependen de este parlamento

a aquella propuesta de ley para modificar la ley reguladora del tribunal vasco de cuentas que realizaba el partido popular y esas mismas razones y esos mismos argumentos nos van a servir para que hoy justifiquemos el voto favorable a la toma en consideración de la

elkarrekin podemos para modificar tres artículos adicionales de la ley no entraré en este momento como tampoco hice

con ampliaciones incluidas y expresaremos en ese momento nuestra posición con las enmiendas que estamos en este momento redactando porque la cuestión en definitiva no ha variado y hoy es la misma que hace tres meses del mes de enero y que no es otra que responder

el funcionamiento del tribunal y cómo adaptamos este organismo a las nuevas exigencias de estos tiempos lo que sí es cierto es que yo espero y deseo que no se añadan

podamos tener definitivamente modificada la ley del tribunal vasco de cuentas muchas gracias eskerrik asko

entonces señor otero por qué nos repetimos tanto pero si está clara ya la opinión de este parlamento

del raca raca cómo es eso de con la burra a brincos es decir eso es para ustedes esta situación en el parlamento vasco una oportunidad recurrente de seguir hablando de un tema debatido hiperdebatido agotado es un tema en el que nos hemos pronunciado

yo sí que entiendo la política de presión la presión política

hemos decidido y además en este mismo periodo de sesiones sobre esta cuestión

por repetirlo todo no se tiene más razón está claro no y por mucho que se empeñen ustedes en anunciar

de la central lo cierto es que estamos más cerca de su cierre que nunca garoña está cerrada y su cierre definitivo está

más cerca que nunca señor otero eso lo tiene que reconocer y lo tiene que ver mire hace un año el señor presidente de iberdrola aseguró a los sindicatos el cierre de la central eso ya hace un año

lo nuevo es galán quiere cerrar garoña y cuestiona la rentabilidad de todo el parque nuclear pide a endesa que renuncie a la reapertura y culpa a las cargas fiscales

en esta fuente de energía iberdrola quiere cerrar garoña

nuclenor reconoce que la continuidad de garoña es inviable económicamente

a los muchos millónes que se han invertido es decir ese es el estado de la situación de la que hemos debatido hace dos meses

y desde luego nosotros no vamos a debatir el informe que han hecho los servicios jurídicos es decir conocemos la competencia de los servicios jurídicos de la cámara y bueno entendemos que han hecho las reflexiones jurídicas que

con este tipo de recursos por decisiones del consejo de seguridad nuclear o la propia que pueda llevar a cabo en su momento el ministerio

que de parlamento lo vuelvo a decir por la especialidad de los servicios jurídicos por la especialización

y por las cuestiones tratadas que escapan por decirlo así al ámbito parlamentario

más especialización seguramente en sus ámbitos jurídicos

letrado mayor seguramente ya le veo yo encargando cursos intensivos de normativa nuclear o de administración de infraestructuras energéticas

actos por otro lado de trámite cualificado incluso en los que hay serias dudas en relación con algunas de las cuestiones pero en cualquier caso el informe de los servicios jurídicos ahí está en cuanto a la legitimación en cuanto a la procedencia de los recursos a realizar pero también hay muchas dudas en cuanto a que sea la cuestión residenciada en este parlamento cuando en

procedente seria el gobierno además hay otra cuestión en relación con la cuestión de fondo

que es la que lleva a la presión política a las instancias administrativas

el gobierno central no puede cercenar unilateralmente un procedimiento administrativo eso iba a perjudicar a todos por el riesgo de sanciones impresionantes que puede llevar

cortar un procedimiento administrativo al que tienen derecho

endesa nuclenor es decir ese pronunciamiento unilateral

igual con su insistencia lo que buscan ustedes es beneficiar a iberdrola y a endesa de que el gobierno central pague importantes

la vulneración del derecho que tienen esas sociedades es que no entiendo a veces el debate empieza a entrar en un bucle

que el gobierno central cercene un procedimiento administrativo qué va a suponer que endesa e iberdrola tengan recibir

en ese sentido yo creo que ahí hay un riesgo que desde luego no podemos correr vamos a actuar vamos a seguir actuando y vamos a pronunciarnos en esta cámara cuando haya algo de verdad nuevo señor otero cuando haya algo nuevo de verdad

es algo normal es algo habitual y se procederá cuando se tenga que proceder

mire yo además creo que lo que está pensando ya todo el mundo es cuándo se produce el desmantelamiento

con esta cuestión hoy estamos más cerca de eso precisamente del desmantelamiento que de cualquier otra circunstancia señor otero es decir

que ahí está la cuestión los servicios jurídicos de la cámara siguiendo con el tema que usted nos refiere

como lo estarán siempre que se den las circunstancias siempre que se analice no hay nada absolutamente nuevo en esta proposición no de ley estamos hablando de una cuestión de fondo simplemente para seguir insistiendo en lo mismo en lo que ya hemos hablado es decir

nuevas que cuando se den circunstancias nuevas pero no usted ha aprovechado un elemento un instrumento jurídico

ya se sabía que se podía proceder en relación con cuestiones que pueden afectar

los servicios jurídicos de la cámara han hecho un trabajo se han apoyado en otras sentencias se ha apoyado en votos particulares del consejo de seguridad nuclear pues bueno pues hay cuestiones que también pueden ser discutibles pero ahí está en relación tiene una serie de decisiones que

la residencia de los recursos en relación con estas cuestiones estaría mejor ubicada en el ejecutivo que en el legislativo pero bueno ya veremos o sea que de los tres puntos que ustedes nos presentan es que no hay nada nuevo el primero es el parlamento advierte que la reapertura sería grave e inaceptable pero cuántas veces nos hemos pronunciado sobre este tema también pero cuántas veces nos hemos pronunciado el parlamento asume el compromiso de emplear

más que el parlamento sería el gobierno pero sobre ese tema también nos hemos pronunciado

ya se sabe de hace tiempo también nos hemos pronunciado sobre ese tema es decir estamos en la reiteración infinita en relación con esa cuestión y
nosotros nos abstendremos muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak rojo anderea zurea da hitza

efectivamente hemos debatido en innumerables ocasiones sobre el tema de garoña así lo dice el señor barrio

pero sí que hay algo nuevo en esta

no es el momento de volver a posicionar a los partidos políticos sobre si estamos de acuerdo o no con la reapertura o con el cierre de la central nuclear de santa maría de garoña

había una duda que era si el parlamento vasco como cámara no como

personarse en el procedimiento administrativo es eso lo que se le pidió a los servicios jurídicos de la cámara y es eso lo que dice

de la misma por tanto era el motivo entiendo por el que bildu planteaba esta iniciativa es verdad que dos de los puntos plantean posicionamientos políticos que ya hemos planteado cada uno de nosotros en esta cámara pero es verdad que el punto de que el parlamento pueda posicionarse

de la opinión de los servicios jurídicos por lo tanto como digo no se trata hoy de reabrir el debate todos sabemos cuál es el posicionamiento aunque reconocerá señor barrio que ustedes no siempre votan lo mismo han votado no han votado sí y hoy votan abstención por lo tanto prueban un poco de todo y así

algo sí cambia cambia el voto del partido popular cada vez que se habla de garoña por lo tanto pues mire usted aporta novedad al debate gracias a la iniciativa del señor otero

de la iniciativa que plantea hoy eh bildu votará a favor porque creemos que debemos cerrar ese círculo ese bucle del que habla el señor

posicionado todos los grupos pero es verdad que este punto que planteamos hoy es una forma de cerrar ese círculo y que en caso de que se le ocurra al partido popular

pues el parlamento vasco haciendo caso a la opinión de la mayoría de los grupos parlamentarios de esta cámara podamos acudir a un procedimiento administrativo y digo se le vaya a ocurrir porque sí señor barrio es verdad aunque sea sorprendente que sí pueda hacer el consejo de ministros el fin de esto y que como se nos decía ayer

que acabemos cerrando todas y cada una de las centrales nucleares

y empezar a trabajar en otro tipo de política energética que la mayoría ni de los vascos ni de los españoles quiere por lo tanto efectivamente eso está en el consejo de ministros

decir qué puede pasar o no con la central nuclear de santa maría de garoña y lo que este parlamento quiere dejar claro es que en caso de que se le ocurra esta cámara hará lo que debe hacer

la sociedad en la calle y lo que le piden los grupos parlamentarios aquí por lo tanto esperemos

no volverá a hablar de garoña ya nunca más porque efectivamente los próximos meses el consejo de ministros y el señor rajoy nos informe de que se acabó la historia de garoña

de las centrales nucleares porque será el punto de acabar con esto pero no sé por qué me da que ya no le quedan votos diferentes lo han votado todo hoy ya se van a abstener a ver si empiezan a escuchar un poco a la sociedad
dejar de aburrirnos ustedes con esto de garoña nada más muchas gracias eskerrik asko

acerca de la necesidad de clausurar o no garoña y aunque la postura era mayoritaria entramos a ese debate preguntándonos quién le pone el cascabel al gato yo creo que si algo quedó claro en ese debate fue

que se aprobó quedó claro que ante la inacción y la dejadez mostrados durante años por el gobierno en esta cuestión

para conseguir el cierre incondicional y definitivo de la central nuclear más obsoleta de europa yo coincido con el señor barrio

por lo tanto es de agradecer en primer lugar la diligencia y el buen hacer mostrados por los servicios jurídicos de esta cámara

han ido urdiendo en torno a la reapertura de garoña y que han quedado al descubierto en este informe

en síntesis el informe confirma que el proceder del gobierno central y de la cúpula del consejo de seguridad nuclear han tenido como objetivo mantener abierta la puerta a prorrogar la vida de las centrales nucleares españolas aun a costa de cometer múltiples irregularidades administrativas

primera irregularidad emitir un informe favorable a la reapertura sin que nuclenor haya ejecutado las medidas de seguridad que el propio consejo de seguridad nuclear

que nuclenor ha difundido en los medios de comunicación las modificaciones de diseño que están pendiente de ejecutar

esta central ni es segura ni ha incorporado las mejoras de seguridad por ejemplo derivadas de las lecciones aprendidas

algo que sí están haciendo el resto de las centrales nucleares españolas pero que garoña aún no ha realizado ciento veintisiete informes han hecho el csn en este sentido sin que hayan sido atendidos la segunda irregularidad grave

una prebenda que el consejo de seguridad nuclear no ha otorgado a ninguna otra central nuclear del estado

todas las autorizaciones caducan en diez años y sin embargo la que se ha concedido a garoña será para los próximos diecisiete años y la tercera grave irregularidad es modificar a petición de la patronal del sector eléctrico unesa y con el único fin de posibilitar esta prórroga indefinida la normativa sobre revisiones periódicas establecida por el propio consejo

pero aún más insólito si se analiza desde el punto de vista del derecho administrativo todas estas maniobras en fin constituyen un claro trato de favor hacia nuclenor y por tanto

y son unas irregularidades cuya publicación en cualquier país civilizado hubiera bastado para que la fiscalía iniciase una investigación de oficio al respeto pero en este país no en este país el poder político y el poder económico tienen lazos muy estrechos

por las cuales circulan favores que pagamos las personas usuarias de la electricidad en cada factura y en cada recibo no obstante lo que sí confirma el informe de los servicios jurídicos es que el parlamento vasco ostenta la condición de interesado

y de titular de intereses legítimos colectivos en materia de medio ambiente sanidad y ordenación del territorio por lo tanto apoyaremos la proposición no de ley de eh bildu porque urge que esta cámara asuma la responsabilidad política que le corresponde y atendiendo a los deseos de la ciudadanía vasca adopte la decisión de recurrir en primera instancia

así como la posterior orden ministerial que con toda seguridad será igualmente favorable a conceder la prórroga de la autorización de explotación hacia

algunos aprovechasen por una vez sus puertas giratorias en beneficio de la ciudadanía

ya que no ha sido así pedimos a los grupos aquí presentes que al menos apoyen está iniciativa y sumen así sus votos al clamor ciudadano que una y otra vez pide en las calles el cierre definitivo e incondicional de la central de garoña y su inmediato desmantelamiento

termino diciendo que en la comparecencia ayer en el comisión de medio ambiente

sentenció que garoña puede ser el fin de la energía nuclear en nuestro entorno o bien el principio de una nueva era de riesgo nuclear en nuestras manos está

egiten saiatuko gara no vamos a presentar ninguna enmienda y vamos a votar favorablemente

son completamente apropiadas hablamos de que el parlamento vasco interponga un recurso contra la resolución de ocho de febrero del consejo de seguridad nuclear que posibilitaba la reapertura garoña y qué tenemos como nuevo en este asunto de garoña pues tenemos un informe de los servicios jurídicos del parlamento vasco que hay que agradecer su densidad y su exactitud y su rapidez en realizarlo

y es también muy sincero y también apunta la posibilidad de que jurídicamente se puedan patinar un poquito y que puede que el recurso no prospere porque apunta las virtudes del recurso pero también apunte los posibles defectos de forma que una autoridad superior

en este punto nosotros vemos dos aspectos el aspecto jurídico y el aspecto político desde el punto de vista jurídico lo hemos dicho vamos a apoyar la presentación del recurso pero sabemos que puede que no prospere es decir que señor barrio si luego no prospera

a presentarlo sino que sabemos que es posible que jurídicamente pueda ser rechazado

incluso desde sus aspectos éticos y morales pensamos

de medidas pacíficas legales o jurídicas para intentar el cierre de garoña es decir que antes de votar que sí a la presentación de ese recurso ponemos por delante también nuestras dudas

de que pueda ser aceptado pero preferimos asumir ese riesgo porque políticamente

pacífica es indispensable para el cierre de garoña aunque no es habitual que una asamblea legislativa se persone como parte interesada en un procedimiento administrativo como lo sería el relativo

ser titular de un interés legítimo con relación al objeto del pleito y a la resolución final que se adopte euskadi tiene competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio así como protección civil transporte sanidad comunicación

atribuye competencia a los departamentos del gobierno vasco en estas

salud transporte obras públicas asistencia social y abastecimiento para el supuesto de que se produjera una emergencia o un accidente nuclear en la central nuclear de garoña donde

para personarse en el procedimiento administrativo como depositario del mandato representativo de los vascos y las vascas

así como también en la representación de los intereses colectivos de la ciudadanía vasca en materia medioambiental materia que se vería directamente muy afectada

existe la posibilidad de formular un recurso primero en vía administrativa y después si ahí se decidiera ante la jurisdicción contencioso administrativa en este caso se trataría

a que predetermina y puede facilitar el contenido de la posterior resolución final del ministerio al fijar las condiciones técnicas de la autorización

de la seguridad nuclear yo creo que lo nuevo señor barrio que tenemos hoy no es que hoy vamos a votar

de este recurso que sí es algo novedoso en el proceso de garoña y

cada día se ve más cerca el cierre de garoña pero no podemos esperando ese cierre

tenemos que estar vigilantes y no podemos dejar de hacer cualquier tipo de medida legal jurídica y pacífica

a que parezca que las medidas de cierre por parte del iberdrola
están cada día más cercanas eskerrik asko

esateko usted dice que cuántas veces nos hemos pronunciado yo no sé cuántas veces se han pronunciado ustedes yo desde luego como decía la señora rojo se han pronunciado de todas las maneras yo

usted está a favor o en contra de la reapertura de garoña su grupo está a favor o en contra de la reapertura de garoña

a mí todavía no me ha quedado claro porque ustedes se van a abstener y esa abstención realmente no sé lo que significa y es curioso que se abstenga

a nosotros a nosotras de raca raca cuando aquí el único que ha hecho raca raca es usted es el único que ha repetido el discurso del dos de febrero aquel día dijo que no había novedades hoy dice que no hay novedades y resulta que todos los grupos hemos venido aquí a decirles que no teníamos ninguna intención de volver a traer el tema de garoña sino que ha sido una cuestión procedimental a lo que nos ha llevado aquí precisamente

precisamente porque había novedades porque había un informe de los servicios jurídicos que nos decía que tenemos posibilidades de actuación y que para hacerlo teníamos que pasar por aquí

en un afán de no querer escuchar lo que se le está diciendo desde el resto de los grupos parlamentarios y desde los propios servicios jurídicos así que me recuerda usted a ese niño al que se le va a reñir y

incorporado cuando precisamente lo que hemos venido es a darle novedades y por otra parte me preocupa también por su parte

a los que pedimos el ocho de febrero que en el plazo de un mes elaborara un informe

el propio mes de febrero nos han hecho un informe que en una primera lectura a nosotros nos ha parecido estupendo y usted dice

pero no solo eso sino que usted dice que a los servicios jurídicos

hacer cursillos y después usted se arroga

la cualidad de no sé cómo decir de letrado mayor

que el resultado de que el gobierno cierre garoña va a derivar en unas cuantiosas indemnizaciones por lucro cesante o por lo que usted quiera contarnos yo creo que y para terminar una última cosa

ha cometido un error que me parece que es importante señalar también

los derechos que tienen las empresas y

no puede hacer eso pues yo le digo a usted que hablando de cercenar el gobierno del estado

en los últimos largos años ya en relación a todas esas pequeñas y medianas decisiones que ha tomado para poder facilitar la reapertura de garoña que es eso lo que ha hecho

lo que ha hecho precisamente es cercenar la posibilidad la capacidad y el derecho de la ciudadanía a expresarse y eso está contraviniendo

y el convenio de espoo en cuanto a los estudios de impacto ambiental transfronterizos y ustedes si siguen con esa actitud nos van a meter en un problema a todos bien porque van a facilitar la reapertura o de garoña o de las siguientes centrales nucleares

por todas las decisiones que están tomando de espaldas a la ciudadanía en ese oscuro órgano que es a día de hoy el consejo de seguridad nuclear así que

acerca del cierre de garoña y le invito a que se sume

de grupos de la cámara que esta vez no somos nosotros los perros verdes son ustedes los perros verdes porque yo creo que también están interpelados ustedes por la ciudadanía

a que hagan cuantas acciones sean necesarias

a lo que ustedes no se están prestando a día de hoy muchas gracias eskerrik asko otero jauna euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

en cada momento y con cada debate que se plantea perfectamente justificadas perfectamente explicadas y ahí está o sea no mezcle todo señor otero no mezcle usted todo

descalificar las actuaciones del gobierno el gobierno lo que está haciendo es respetar el trámite

y está respetando los procedimientos legales porque hay reglas del juego hay que cumplir las leyes las normas las normativas hay que atender y estudiar los dictámenes de los organismos especializados y asesores y hay que seguir por ahí

que le acusaba yo de que no hay cosas nuevas pues claro que no hay cosas nuevas ustedes están en el raca raca y en con la burra a brincos que le decía al principio del principio de siempre

yo sí que es el que ha traído una novedad aquí la novedad es lo que ha dicho la empresa la novedad es lo que dice galán en relación

la novedad es que nuclenor reconoce que la continuidad de garoña es inviable económicamente

el informe de los servicios jurídicos es un planteamiento jurídico que va en relación con lo que este parlamento ya ha ido exigiendo en el parlamento se lo había hecho al gobierno en relación con íbamos a estar preparados para los recursos o podíamos estar preparados para los recursos ante las decisiones

ese es el elemento fundamental señor otero yo creo que la novedad es precisamente como le decía antes que garoña está cerrada y además la novedad es que estamos más cerca del cierre definitivo de lo que hemos estado nunca más cerca del cierre definitivo o sea que eso a usted verdaderamente tranquilo y parece ser que eso de los recursos igual además se neutraliza en sí mismo no hay novedades señor otero en el trámite político en el trámite jurídico cuando las haya pues hablaremos de ese tema pero en este momento no están así además yo le he oído perfectamente le he oído perfectamente usted ha dicho que yo me tapo los oídos no le he oído perfectamente y por eso

en cada pequeña dimensión de este debate de esta reiteración yo también le explico perfectamente lo que pensamos y lo he dicho también en mi intervención

del medio en relación con votar sí no abstención vuelvo a decir así

y votar sí no abstención vuelvo a decir lo que hemos votado lo hemos explicado

ahí están es decir pero que me lo diga el partido socialista que me lo diga el partido socialista obrero español que garoña está abierta

garoña está abierta porque zapatero impulsó una prórroga hasta dos mil trece por eso está abierta garoña

la abrió la reabrió o sea que en ese sentido a nosotros la coherencia

no nos la pongan en entredicho señora rojo en relación con este tema

el cascabel al gato que usted hablaba parece ser que finalmente

los propietarios de la central y cuando con todo este procedimiento vuelvo a decir con todo este procedimiento usted alegremente ha hablado de irregularidades administrativas vamos a ver por qué dice usted eso ha denunciado usted o ha denunciado alguien irregularidades administrativas las ha recurrido a mí no me consta ningún procedimiento

procedimiento judicial abierto ningún acto ni siquiera judicial en relación con esta cuestión cuando se habla

un determinado procedimiento y más que un procedimiento seguramente no le gustará la cuestión de fondo o en relación pues eso no se puede despachar

y supongo que habrá que denunciarlo

no hay nada nuevo nosotros ya nos hemos pronunciado muchas veces sobre la cuestión de fondo reiteradamente y de una manera clara es decir yo creo que

podrán actuar los servicios jurídicos de esta casa como lo podrán hacer los del gobierno vasco pero en ese momento valoraremos esa circunstancia pero ahora señor otero

retintín el estribillo igual dentro de dos meses así antes de finalizar el periodo de sesiones tenemos alguna otra
importante iniciativa en este sentido de su parte muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

sí gracias presidenta mire señor barrio es que no iba ni a salir ni a bajar ni a coger el micrófono ni a nada unos estamos con la burra a brincos y es que ustedes no pueden estar con la burra a brincos en nada

lo explica efectivamente porque ustedes creen que el papel la tribuna y los parlamentarios lo aguantamos todo pero no señor barrio

el tema de zapatero debieran mirárselo tienen un problema que creo que merece atención

esta parlamentaria en el debate anterior que creo que la parte mía usted sí que se la saltó queriendo quitarme de en medio no se ha debido de leer el acta entera

lo expliqué efectivamente se prolongó la vida de la central cuatro años

y este es el motivo por el cual este parlamento ha vuelto a debatir garoña

en este tema en la comisión parlamentaria y nos quieren convencer de algo que no es real

para pretender explicar que gracias parece ser a iberdrola y no al partido popular la central parece que se va a cerrar y tenemos que estar contentos

señor barrio pero no exime la responsabilidad del gobierno de rajoy

y usted lo sabe porque desde luego este parlamento creo

pretende hacer política a raíz de lo que digan las empresas

llevan defendiendo desde que rajoy llegó al gobierno que la vida de las centrales nucleares

hasta que ser indefinida y hoy nos explica que el motivo para que garoña vaya a ser cerrada es que el señor galán ha dicho que como cuesta mucho dinero o le eximimos de los impuestos a las empresas o parece que hay que cerrarla y eso es lo que nos ha venido usted a contar aquí

porque aquí todos los que hemos venido a hablar hemos dicho hoy no toca hablar de central de garoña sí o central de garoña no hoy lo que venimos a decir es

podía comenzar un procedimiento administrativo y eso es lo que votábamos hoy y usted con la burra a brincos en eso sí

a raíz del cual un día votan sí un día votan no y un día votan abstención y como le digo

política e ideológica no a la energía nuclear ustedes depende de quién esté sentado en esa bancada antes estaban allí ahora están allí

votan una cosa diferente álava y euskadi no quieren la central de santa maría de garoña

y no la quiere independientemente de lo que diga el consejo de seguridad nuclear y usted señor barrio sabe igual que yo que es una decisión que se toma en el consejo de ministros

yo lo que le digo es que tomen una decisión pero una el cierre

pasa más inadvertido y parece que el partido popular defiende otra cosa por tanto no nos enrede usted a nosotros hay que tener una posición una

hizo una cosa pero es que ustedes es el segundo gobierno que llevan están haciendo nada desde luego nada que respalde la opinión ni social ni política de los ciudadanos vascos por lo tanto en fin y como le digo y para terminar

porque creo que desde luego los socialistas yo dormiré mucho más tranquila y creo que ustedes empezarán a tener un problema menos de todos los que tienen

porque en fin como le dije un día y se lo dije a usted además menos mal que existió porque si no habría que inventarlo eskerrik asko

usted es abogado yo no entonces supongo que usted tendrá

cómo puede ser que cuando un consejo de seguridad nuclear hace ciento veintisiete informes diciendo que hay que acometer una serie de medidas de seguridad y por escrito dice que no se podrá autorizar la reapertura si no se ha acometen esas mejoras y aun así este último informe

pues obviamente eso es una incongruencia palmaria donde hay informes contradictorios

un consejo de seguridad nuclear tiene una normativa pongamos que este parlamento tiene una ley aprobada y acomete la modificación de la ley y cuando esa ley está en la ponencia de modificación al gobierno se le ocurre aplicar esa ley la resolución es nula

por lo tanto no me lo estoy inventando lo que han venido a decir los servicios jurídicos de esta cámara es que efectivamente la resolución o el informe del consejo de seguridad nuclear

claro que no hay ninguna sentencia si nadie lo recurre cómo va a ser sentenciado en contra y lo que están diciendo los servicios jurídicos y lo que está proponiendo eh bildu es que efectivamente hagamos el recurso para que en un momento dado haya una sentencia contraria eso no quiere decir que y lo vuelvo a repetir en otro país

estaría siendo investigada lo vuelvo a decir y lo vuelvo a repetir posiblemente por la fiscalía por posible trato de favor porque es así ahora eso

palmarias y evidentes en el informe que ha presentado la cámara nada más eskerrik asko becerra jauna

nos sentimos dichosos de haber podido formar parte de este grupo de gente

para emprender el camino hacia el horizonte de la dignidad humana

en la plaza circular de bilbao lo recuperamos porque nos sentimos reconocidos en él como nos sentimos reconocemos en sus veintiocho años de existencia

la que plantaba cara a los asesinos la que jamás calló ante cualquier vulneración de derechos aquella que concitó el respeto mayoritario de los representantes

esa es la sociedad civil de la que formamos parte porque nos sentimos civiles y ciudadanos una sociedad civil cuya implicación

y a la que ahora se suman otras agrupaciones civiles para rematar lo que estaba pendiente ojalá este entusiasmo actual en participar en el cerrojazo al terror hubiese sido compartido también cuando ponerse un simple lazo azul

pero aquel día de dos mil trece muchos exhibimos la chapa de lortu dugu muchos incluso la guardamos porque sabíamos que quedaba tarea pendiente

con las que aún simular cualquier idea sobre su influencia en la vida de los vascos y en las cosas que íbamos decidiendo en las instituciones nada de eso ha ocurrido nada de lo que defendieron quienes empuñaron las armas ha ocurrido euskadi es lo contrario a aquellos que quisieron imponer

que piensan como quieren y organizan sus vidas como ellos deciden euskadi es una sociedad que hace mucho amortizó

y un día eta acosada por las fuerzas policiales acosada por el menguante apoyo social que le sirvió como único justificante

capucha puesta y arrano al fondo escenografía para un final que los socialistas siempre recordaremos

había un gobierno socialista en españa y había un gobierno socialista en euskadi un gobierno socialista vasco que expresamente tan solo dos años antes había sido puesto en la diana de los terroristas todos sus miembros y todos los que se dignaran a colaborar con aquel ejecutivo cómo no vamos a recordar

y sabemos que no llegamos solos pero no podemos pasar por alto ese dato

quienes vivimos en primera persona que el cerco se estrechaba que estábamos más que nunca en el punto de mira

y pusiese su conocimiento al servicio de la sanidad pública o de la educación pública o de la estrategia industrial o de las políticas de protección social quienes vivimos eso entonces en primera persona

cambio la vida de todos los ciudadanos de este país de nuevo aquí nuestro agradecimiento más sincero a quienes se atrevieron a quienes no se escondieron

incluso de la suya propia de su propia vida porque aquel día del dos mil once fue el primero de nuestra historia reciente en la que no hubo ya ni un solo ciudadano ninguno

a pasear al perro a improvisar una tarde de sábado aquel fue el primer día y sin embargo cinco años y medio después eta sigue conservando armas no hay nadie que pueda entender que quién ha dicho que no va a volver a matar tenga armas hace mucho que eta está desarmada moral y socialmente y ahora va a continuar lo que había dejado pendiente y de verdad para los socialistas no es una cuestión menor

queremos que haya una nueva reparación a las víctimas queremos que se abra una ventana para que de esas armas

y que sus familias puedan cerrar su duelo que sepan quienes fueron los culpables y eso solo lo va a determinar la justicia en cuyas manos debe culminar el proceso abierto por eso esta iniciativa por eso esta implicación socialista en acabar

la de este parlamento en el que estamos la de este gobierno en el que participamos porque liderando gobiernos anteriores conseguimos lo más importante

sin que hubiera ni una sola grieta en el estado de derecho ahora participando del gobierno sin que haya tampoco ni una sola grieta en el estado de derecho

donde la ley lo prevé los socialistas hemos sido responsables y leales en el pasado lo somos en el presente y lo seguiremos siendo en lo que queda pendiente no es nuestra responsabilidad el futuro de las armas la responsabilidad es de quién las tiene que entregar y de los jueces que las tienen que investigar

velar para que ese procedimiento sea seguro y no es nuestra responsabilidad el rastro de dolor de ese medio siglo protagonizado por eta es responsabilidad de eta

ese daño tan injusto como inútil pero es nuestra responsabilidad como partido y en este caso además como partido del gobierno contribuir a acompañar y a reparar a cada una de las personas de este país que ha sufrido bien directamente a eta o bien a quienes con la excusa de eta han visto vulnerados sus derechos humanos

no pretende que se planteé como un debate es verdad que el formato propicia el contraste de opiniones

pero creíamos que como está en nuestro acuerdo de gobernabilidad como primero de los compromisos en materia de derechos humanos para esta legislatura teníamos que ser parte activa

y pensábamos como está justificado también que este parlamento

debiera de pronunciarse sobre esta necesidad sobre la necesidad de que no se prepare un acto de reivindicación de eta sino que se materialice un único acto de desarme completo unilateral definitivo y verificado un acto legal donde quien hasta ahora sigue fuera de la ley deposita en quienes hacen cumplir la ley lo que les queda como amenaza de la sociedad

a la definitiva desaparición de eta a la que le debe acompañar una reflexión crítica y un reconocimiento del daño causado

reconciliar con las víctimas pero que estas víctimas necesitan para que quienes fueron señalados políticamente como traidores al pueblo vasco vean reconocido públicamente que nunca hubo mayor traición que la eliminación del que pensaba diferente del que se negó a colaborar económicamente con ese aniquilamiento y llegará un día

sin debate sin cuestionamiento mediante declaración institucional diga todos a una que en este país nunca jamás nadie debió matar extorsionar

ni por razón de estado que ningún torturador ni ningún terrorista debieron ser asesinados porque ambos juzgados que matar estuvo mal y que reconocer ese mal pasado es la mejor contribución

ninguna justificación ni ningún acompañamiento ni político ni social para repetir lo peor de nuestra historia como vascos los socialistas vamos a trabajar para que llegue ese día y lo vamos a hacer

como hoy desde la responsabilidad hacemos lo que está en nuestras manos y desde la más escrupulosa legalidad para favorecer que eta culmine lo que tiene pendiente y está bien que lo haga pero no merece ni un solo aplauso nada le debemos y ella nos lo debe todo

debió hacer y como han dicho los gobiernos de españa y francia nadie puede poner impedimentos para que armas que están en manos de una organización terrorista pasen a manos de la justicia para los socialistas es mejor esta situación que la de los cinco años anteriores y sobre todo que la de los cincuenta años anteriores sin ninguna duda pero

por recuperar la vida hoy nos queda repetir que no hay cesiones

que es desaparecer y facilitar que tantas familias puedan completar su duelo

los responsables de su sufrimiento porque son esas familias las de los ochocientos cincuenta y ocho asesinados las de los miles de heridos la de las decenas de miles de amenazados las que tenemos que estar presentes en ese momento es el primer recuerdo que tuvimos al confirmar que eta ponía fecha

el recuerdo a agentes policiales a funcionarios de prisiones a compañeros de nuestro partido muchos demasiados y de otros partidos aquí presentes

a quienes fueron asesinados a quienes fueron extorsionados a quienes se tuvieron que exiliar y a esa gran mayoría que a pesar de sabernos señalados nos quedamos en este país para que el terror no venciera a la libertad ellos y ellas

los obreros y obreras de la memoria los arquitectos de la convivencia y hoy de nuevo los socialistas vascos nos comprometemos expresamente

desde la legalidad y sin condiciones y reiteramos nuestro compromiso con el trabajo activo

bases para deslegitimar el terror para que quede claro a todo el mundo que jamás hubo razón política ni razón de estado para que nadie

a la vida y a la integridad y para que las víctimas sean reconocidas y reparadas todas desde la responsabilidad desde la lealtad y volviendo al mensaje

nos sentimos también orgullosos de haber formado parte de la sociedad civil de este país

a la postración ética para avanzar hacia la dignidad humana porque pensábamos que euskadi lo merecía como hoy nos merecemos que eta deje lo que tiene
en manos de la justicia y se disuelva eskerrik asko pastor jauna

señora presidenta muchas gracias señor lehendakari consejeros consejera señorías

lo que pasa es que las manifestaciones que han hecho algunas de las cuales yo comparto

no fuimos aquí en el país vasco el país vasco no creó a eta no le debemos nada comparto también quiénes fueron los que aquí han traído la paz y la sociedad civil que supo resistir el problema es que nada de estas afirmaciones que han realizado se contiene en la declaración de la proposición que han traído hoy aquí a discusión y que yo no puedo compartir

al texto que ustedes han traído al debate de la cámara texto que encuentro

intención con la que se trae en este momento aquí en vísperas de que se vaya a llevar el desarme anunciado por eta el próximo sábado en primer lugar me parece una posición humillante para un parlamento

que se dirija a una organización terrorista instándole como si fuese un factor político más como si fuese un agente político normalizado como se insta a una institución pública

creo sinceramente que los que estamos representados en este parlamento no lo estamos solamente por haber recibido el voto de los ciudadanos no estamos solamente porque estamos representado a esos ciudadanos también nosotros somos representantes

de la dignidad de esa democracia que sienten los ciudadanos somos representantes de eso entonces cómo podemos poner al parlamento en pie de igualdad con una organización terrorista que no ha causado más que daño y no ha causado más que dolor en esta tierra

sobre lo desafortunado que es instar ni siquiera pedir ni siquiera exigir

por qué se dice también que hace falta una verificación llevada a cabo por observadores internacionales en un proceso de desarme cuando la verificación

a las fuerzas y cuerpos de seguridad a los jueces a quienes tienen la información necesaria para poder llevarla a cabo a los que siempre han estado verificando todo lo que tiene relación

de esa organización terrorista cómo se puede hacer un reconocimiento señor pastor contrario exactamente a las palabras que usted ha manifestado aquí hace poco en sus discursos a esa sociedad civil a la que se refiere esta proposición a esos llamados

cuál es su trayectoria cuál es su currículo dónde han estado siempre defendiendo apoyando también

y finalmente se invita a los gobiernos de españa a los gobiernos de francia que son dos naciones democráticas que se sustentan sobre el estado de derecho a que coadyuven al proceso yo quiero decir que es evidente que ningún gobierno se opone a la en relación con la actividad

y que para todos nosotros es bueno que eta asuma su derrota y es bueno

no puede obtener absolutamente ningún precio a cambio y que en ese sentido y es lo que yo pienso lo que va a ocurrir

es una escenificación de la rendición de esa banda terrorista pero a mí me hubiera gustado que esta proposición lo dijera que esta proposición fuera exigente

definitivamente de nuestras vidas que reconozca el daño que ha causado que naturalmente pida perdón que colabore con la justicia para esclarecer los crímenes que están todavía sin resolver hace pocas fechas murió fernando altuna era amigo mío a su padre lo mató eta

él no pudo vivir sin haber sido reparado sin haber recibido esa justicia por eso murió

de la que parece son esas armas las que se emplearon con estos crímenes

necesitan conocer me hubiera gustado que se pidiera eso y me hubiera gustado también que este parlamento fuera capaz de condenar no solamente el ejercicio pasado de la violencia no solamente decir es que matar estuvo mal hay que condenar

que sostenía el uso de la violencia al final matan las armas matan esos muchachos

o qué mata mata la idea mata la voluntad política de imponer un proyecto totalitario en euskadi de eliminar físicamente al adversario político eso es lo que mató

de esa ideología que llevó a lanzar muchachos a empuñar las armas y a destrozar sus vidas y las vidas de los demás y causar el daño el dolor que todavía

pero nada de eso se contiene tampoco en esta declaración ni siquiera un reconocimiento de que hubo una parte de la sociedad civil que fue valiente hoy esta mañana estaban reunidos

son personas intelectualmente comprometidas personas informadas arriesgaron su vida alzaron la voz en un momento en que era muy difícil hacerlo y no son de mi partido

en el partido socialista pero sí son representantes genuinos de una dignidad y el manifiesto que han leído hoy a mí me parece un manifiesto por la dignidad

entonces la pregunta que yo me hago es por qué es necesario esta proposición

en una cámara que tiene efectivamente que representar ese sentimiento de dignidad que es mayoritario en la sociedad vasca por qué es necesario

incorporarse de alguna manera o hacerse eco

con que eta quiere camuflar la derrota que está sufriendo y camuflar también el hecho de que no ha obtenido absolutamente nada porque nadie ha negociado con ellos

lo están haciendo ustedes por cálculo político yo me he preguntado en esta tribuna

eta duró tanto tiempo porque eta siempre contó con apoyo político y con apoyo social eta empezó a morir de inanición

ese apoyo político y el camino del desarme social de eta no está terminado

y yo entiendo que se le quiera rescatar pero a qué precio se quiere rescatar esa parte de la sociedad

de eta y de sus crímenes a qué precio la legislatura ha empezado aquí rebajando el suelo ético la exigencia a eh bildu muchos de cuyos miembros vienen de ese pasado para que pudieran incorporarse a una ponencia de paz y memoria del parlamento y ahora esto aplaudir decir eta es un actor

y ahora entrega las armas porque tiene que asumir su rendición no podemos pagar esos precios

y por eso nosotros no podemos apoyarlo me inquieta dónde va la legislatura creo que no es el camino realmente de avanzar en ese desarme social

ayer hubo una fotografía en la que nosotros no estábamos no nos invitaron no hubiéramos acudido

muy satisfecho y dijo ha sido un buen día para unos y ha sido un mal día para otros

nosotros hemos tenido francamente días mucho peores

siempre supimos mantener nuestra posición la hemos compartido

en aquellos días muy malos pero para él era un buen día porque había conseguido establecer un cordón sanitario en torno al partido popular porque había conseguido ser él el que legítimamente es aceptado en una imagen

y porque algunos de los que más han sufrido algunos de los que más han peleado

en san sebastián no tenían sitio en esa foto porque conseguía sacar de esa imagen de ese símbolo

de que eta no haya obtenido absolutamente nada después de cuarenta años

y él estaba satisfecho y le parecía que eso era un buen día

yo no me siento solo siento de verdad el respaldo de una mayoría social que quiere esa dignidad y siento también que cuando pasen los años

cuando pasen las generaciones en el futuro quién lea el diario de sesiones del propio debate que estamos teniendo hoy de los debates que mantenemos en esta cámara con qué posición se va a identificar dónde va a encontrar que está el relato razonable no en la comprensión de eta no en el cálculo político de decir oye que estos tienen dieciocho diputados

no vamos a ofender a molestar vamos a olvidar vamos a pasar página no en ese cálculo político de verdad búsquenlo en mantener sus convicciones

yo lamento voy terminando señora presidenta yo lamento también

cómo es no autoexcluimos de la vida política en el país vasco

que también esto ha sido a pocas semanas de pactarlo entonces el discurso era

pero creo que también hay que reflexionar sobre eso los adversarios políticos tienen otras ideas

y nadie se excluye de la vida política por tener una idea distinta

destruir colabora a camuflar la derrota sin condiciones sin precio y la rendición

quien crea que este sábado hay algo que celebrar y se equivocará quien crea que gana o vence alguien que no sean las víctimas o

quienes quieran llevar la disputa por el relato a este sábado este sábado

ni siquiera lo hizo cuando eta declaro el cese definitivo de la violencia este sábado

será difícil porque en la mente de todos y todas nosotras estarán presentes

los miles que fueron heridos los miles que perdieron a un ser querido

personas que vivieron amenazadas chantajeadas o estuvieron en su punto de mira

que han sido décadas de violencia lo injusto que fue el daño causado lo injustificado de creer que la violencia era una estrategia aceptable este sábado la sociedad vasca tenemos una ocasión para avanzar en eso

la deslegitimación social de la violencia que no es otra cosa que entender que la violencia nunca debió darse que nunca hubo escusa ni justificación para ella que matar torturar secuestrar

o extorsionar estuvo mal y que estuvo mal desde el primer día por eso mismo este desarme no llega tarde cinco años llega tarde cinco décadas esa deslegitimación de la violencia es más necesaria que nunca cuando se está precisamente

que hicieron posible la violencia por eso este sábado será un momento para que de forma colectiva revisemos críticamente el pasado un pasado

tristemente se impusieron por todo esto el sábado es un día para que todos y todas reflexionemos serenamente reflexionemos sin reproches y sin ajustes de cuentas pendientes de que es lo que ha sucedido estas décadas en nuestra tierra este sábado tocará hablar de eta pero somos conscientes de que

más aún ni tan siquiera el desarme de la propia eta concluirá con la entrega de las armas en nuestro país la violencia ha tenido una dimensión directa durísima

pero también hubo una violencia cultural una violencia que empapó el día a día lo cotidiano de la convivencia hasta fracturarla en muchos casos esa violencia tenía que ver con la palabra con actitudes y comportamientos esa otra violencia también hay que desarmarla esa otra violencia también tenemos que deslegitimarla y si me permitís un pequeño

menos evidente pero igualmente dañina es tan importante o más que la primera hoy hemos llegado a este punto a este hito guste más o menos es un hito por múltiples razones es evidente

que la disputa por el relato de este fin de la violencia ha hecho que este desarme llegue tarde si es que un desarme no llega tarde siempre ha hecho que este desarme haya vivido capítulos difícilmente explicables y difícilmente aceptables capítulos que en ocasiones cayeron en lo ridículo es cierto

no podemos dejar pasar por alto que la principal y primera responsabilidad del desarme es eta fue ella la que se hizo con las armas y por lo tanto es ella

pero no es menos cierto que los gobiernos y me refiero fundamentalmente al gobierno español tenían el deber político e incluso moral de hacer que ese desarme se produjese cuanto antes y en las mejores condiciones posibles de seguridad y de inmediatez y ha sido esta falta de diligencia de los estados la que ha llevado a una alternativa tan particular como forzar a que sea la sociedad civil

sinceramente creo que todos imaginábamos un desarme en otras claves pero este es el que tenemos este es el posible y no va a ser por falta de responsabilidad política rigor

que se malogre dicen que en ocasiones lo mejor es el enemigo de lo bueno

pero desde cada una de las fuerzas políticas que participamos en elkarrekin podemos no vamos a escatimar recursos y compromisos para facilitar su desarrollo y para asegurar dos cuestiones fundamentales que el desarme es unilateral y que no tiene ningún tipo de contrapartida

importantes para las víctimas precisamente las personas que más han sufrido por estas armas este sábado no puede haber una demostración de fuerza por parte de eta

no puede ser que las armas cobren un protagonismo que debe ser el de las víctimas y el de la convivencia este desarme es unilateral y no tiene contrapartidas

eta no va a lograr ningún objetivo político ni tan siquiera va a tener ni nuestro agradecimiento ni nuestro reconocimiento abandonar las armas no es algo heroico

es simplemente asumir como absoluto ético y político los derechos humanos y la dignidad inviolable de toda persona esto es tan básico que no merece premio alguno decía que las víctimas deben ser las protagonistas

pero también de las que han hecho otras para las víctimas este sábado debe representar un avance en su derecho a la verdad

la entrega de las armas este sábado puede permitir que la autoría y circunstancia de algunos de estos atentados

que eso es algo positivo creemos que es un derecho básico de toda víctima pero sobre todo este sábado tiene que quedar clara otra cuestión

habrá dado otro paso más y lo habrá dado gracias al esfuerzo de la sociedad civil lo habrá hecho concitando un apoyo político sindical y social desconocido en mucho tiempo la foto de ayer mismo con la práctica totalidad de los partidos

un avance que vamos a trabajar por consolidar en el futuro sin embargo es innegable y además lo acabamos de ver que en esa foto faltaba una fuerza que es el partido popular

llamamientos sinceros humildes y respetuosos para que se sumen a la ponencia de memoria y convivencia hoy les queremos hacer llegar de nuevo el mismo llamamiento

a vuestras legitimas posiciones os estamos llamando a ser capaces de sentarnos en la misma mesa y poder debatir y llegado el caso a alcanzar acuerdos

es evidente pero queremos volver a deciros que no nos sobráis en euskadi

y que el sufrimiento que habéis padecido junto con el sufrimiento que han padecido también otras fuerzas políticas que hay en esta cámara y en soledad durante no poco tiempo no nos es indiferente

que el proceso de construcción de paz no nació con la declaración del cese de violencia de eta

y decía que no acababa con este desarme ni tan siquiera con la disolución de eta terminará cuando hayamos sido capaces de sentar una convivencia plenamente democrática en euskadi cuando la pluralidad política identitaria de nuestra sociedad del ser vasco

cuando nadie crea que la violencia es un recurso frente a los conflictos propios de cualquier sociedad compleja

una verdadera cultura de paz haya permeado hasta el último rincón de nuestra sociedad

será imprescindible que toda violencia sea del tipo que sea la ejerciese quien la ejerciese sea deslegitimada y los derechos a la verdad la justicia y a la reparación

sin excepción alguna sean reconocidos termino expresando un compromiso solemne de las fuerzas políticas a las que represento un compromiso solemne en el lugar más importante de la representación de la ciudadanía vasca en elkarrekin podemos vamos a dejarnos la piel

dialogaremos y llegaremos a todos los acuerdos que sean necesarios para hacerlo posible

teniendo siempre como principios los derechos humanos y la dignidad de las víctimas razón por la cual hoy votaremos a favor de la proposición traída

ere el sábado ocurrirá el desarme de eta

en la iniciativa que hoy debatimos son varios los agentes que están llamados a coadyuvar en este paso necesario para avanzar

ahora esa palabra y esa voluntad se van a hacer efectivas pasará de las palabras a los hechos a partir de este mismo sábado eta se convierte en un actor desarmado y una organización inocua sin riesgo para nada y para nadie y desde mi punto de vista esta es una aportación de gran valor

nos están repitiendo de garantías de no repetición de vulneraciones de derechos humanos no es la única aportación que se debe de hacer efectiva

existen otras expresiones de violencia otras conculcaciones de derechos humanos que también hay que garantizar no volverán a producirse como recientemente además nos recomendaban amnistía internacional en esta misma cámara

una aportación importantísima un gran paso hubiese sido lógico que a esa voluntad también hubiesen respondido en términos positivos otros agentes concretamente los estados español y francés

diría que como ya no se les espera para facilitar o para actuar en positivo sí al menos esperamos que no pongan más obstáculos o dificultades

y así lo reconocemos en la propuesta que se va a votar hoy se ha activado la sociedad civil se ha puesto en marcha se ha puesto a la labor

de resolución tengo que reconocer que siempre he tenido cierta envidia sana de lo que estaba ocurriendo en ipar euskal herria la amplitud la pluralidad política la altura de miras de los agentes políticos con que estaban respondiendo a las nuevas oportunidades abiertas

sociológico todo el espectro político con excepción

de agentes sindicales y políticos que nos trae el reflejo de esa amplitud y de ese pluralismo de iparralde

establecer cierto paralelismo incluso en las ausencias aquí

también hay quien efectivamente ha preferido autoexcluirse de buenas decisiones de posiciones razonables y de acuerdos amplios en tercer lugar era preciso y así lo reclamamos la actuación de personas organismos instituciones internacionales de reconocido prestigio que aportaran su conocimiento oficios su ánimo su paciencia incluso su inspiración para poder avanzar en positivo y de manera constructiva

que el proceso se ha culminado eficazmente por último era preciso certificar la aportación que iban hacer las instituciones públicas vascas que por medio de la declaración apoyar coadyuvarán a este objetivo compartido todos los instrumentos están sobre la mesa todos los ingredientes están sobre la mesa

el sábado se va a completar el proceso de desarme de eta ante lo cual quiero mostrar la satisfacción de euskal herria bildu batzuk

pero sí me parece importante hacer algunas reflexiones quién podía pensar hace quince años o diez u ocho que podíamos estar en el momento que estamos hoy

de cese unilateral de la lucha terrorista por parte de eta

un desarme unilateral por parte de eta que se vaya a producir espero que cuanto antes una disolución lo más rápidamente posible probablemente nadie de los que estamos en esta sala tenía posibilidad alguna de carácter mental

una realidad como la que tenemos ahora creo que eso es lo más importante que tenemos hoy encima de la mesa más allá de matices de lenguajes de discrepancias de posiciones políticas

poner todos en valor porque en fin creo que el tema lo merece y es importante no se hacía un llamamiento a los gobiernos

que es eta pero hasta los propios gobiernos francés y español

de perfil bajo para no estorbar para que este tema se produzca señor alonso su propio gobierno mantiene una postura

en esta ocasión creo que es un elemento importante para poner encima de la mesa usted hablaba de algunas personas intelectuales y víctimas que se habían reunido y que eran representantes de la dignidad democrática del orgullo yo coincido con ello pero también ustedes

y miles y miles de ciudadanos anónimos y no tan anónimos que hemos sabido aguantar

nosotros también somos dignos y nosotros también somos creíbles cuando hacemos una afirmación como la que hemos querido hacer aquí

hemos compartido y compartimos en muchas cosas la misma trinchera y creo que eso es importante usted hablaba de la foto quiero acabar con esto

hubieran estado también ustedes porque el hecho de que el señor otegi al que usted nombraba

no quiere decir que nosotros nos hayamos ido a los postulados del señor otegi no no al revés es el señor otegi el que ha ido a compartir

de fuerzas políticas no le dé usted un premio que no le corresponde en este momento político señor alonso eskerrik asko pastor jauna egibar jauna zurea da hitza

quien dice que aunque algunos se empeñen en negarlo

y en definitiva lo de las armas es una simple anécdota porque en definitiva es solo hierro y eso lo ha escrito el ex diputado general yo ante semejante reflexión alguna respuesta también reflexiva

la satisfacción de que por fin se materialice la decisión una decisión que significa desarmarse no utilizar las armas y las armas

motivación política pretendían no solamente hacer daño que lo conseguían sino también condicionar la política por lo tanto hay

por eso hacía la pregunta de por qué se ha dejado la lucha armada

el razonamiento es importante para haber llegado a esa conclusión y por qué ahora sí y no hace diez quince o treinta años

una respuesta a estos interrogantes podrá dar satisfacción pues no sé si a la ciudadanía en general a las víctimas

cuando se toman determinadas decisiones que son estratégicas que conllevan incluso una afección personal y si la política

la cualidad de expresarse con mucha claridad

consigue poner en posición incómoda a aquellos que llegando a algún acuerdo con usted realmente es verdaderamente incómodo para mí escuchar esto en esta cámara y no decir nada y que se nos anuncia a partir del sábado eta es una organización inocua el

por qué había ocurrido esto pero no quiere aceptar mi tesis que es la realidad

esta verdad es la verdad y es muy significativa y muy significativa también para nuestras vidas señor pastor

los mitos que se derrumban primero eta no era invencible cuando yo era joven me decían no se puede ganar a eta es invencible

y decían habrá que negociar habrá que ceder habrá que llegar a algún tipo de entendimiento

eta no es vencible no se le puede derrotar por medios policiales eso nos decían a nosotros

oiga aquí en el país vasco hubo gente que pensó que naturalmente

y la noticia de ahora y la noticia de la que es expresión el sábado es que la democracia ha ganado al terrorismo

y el vencedor es la democracia y esta cámara no puede hurtar esa victoria

que se movieron ni al estado de derecho que es el que acorraló a los terroristas pero eta no es una organización inocua porque

mataban las armas mataba el que empuñaba las armas mataba la idea que quería imponerse

esa idea mataba entonces nosotros tenemos un camino para repudiar esa idea

porque esa idea que sigue empuñando eta organización

y por tanto no hay tiempo para la comodidad señor pastor ya está ya hemos terminado el trabajo ya podemos estar cómodos escondemos entonces

a ver qué nos van a decir no es tiempo de comodidad queda mucho trabajo por hacer esto no termina eta se va a disolver ni siquiera terminará cuando se disuelva eta son muchos años

que está en la comprensión de lo que ocurrió o que está buscando coartadas para justificar por qué pudo ocurrir eso en una sociedad civilizada madura avanzada como es la sociedad vasca o que todavía le cuesta muchísimo

o que tiene una herida porque tiene una herida porque sufrió eso no se cierra en dos días

o en el discurso absolutamente rechazable del señor arzuaga que quiere convencernos

pero qué es eso por tanto yo creo que nos queda mucho trabajo por hacer y que hoy echamos un paso atrás

pero no que nosotros le demos esta satisfacción esta mañana esta satisfacción de víspera a título póstumo a una organización que ya

absolutamente vencida no sé si esto le empaña

es incomprensible que hayan tardado cinco años después de que dejaron de matar en entregar las armas

sigue siendo incomprensible pero le digo una cosa no espere usted absolutamente ninguna contrapartida ningún favor

tendrán eta tendrá lo que le corresponda con acuerdo a la ley y por tanto eso es lo único que puede esperar y además es lo único
que pudo esperar desde el mismo momento en que cometió el primero de sus atentados muchas gracias eskerrik asko alonso jauna elkarrekin podemos

modukoa da un par de menciones porque se están abriendo muchas expectativas en torno al esclarecimiento de los casos con las armas que

a aparecer el sábado y yo me hago algunas preguntas como por ejemplo en todos esos operativos policiales que han ocurrido en los últimos años en los cuales también se han incautado algunas armas a eta

han servido para esclarecer porque creo que se están abriendo continuas expectativas en torno a esto y me parece preocupante y comparto una idea que precisamente ayer le escuchaba

cuestiones de conflictos que decía que sería incomprensible pretender represalias ante quien voluntariamente se está

sino que se está buscando precisamente imponer castigo una actitud de venganza que desde mi punto de vista dificulta también el que en este pueblo se establezca la convivencia nosotros siempre hemos solicitado una comisión para la verdad

no le tememos a la verdad pero también hago otra pregunta si se habla de esclarecimiento

esclarecer el paradero de josé miguel goikoetxea naparra infructuosamente buscado esta misma semana en algunos parajes en las landas

los cuatro guardias civiles acusados de torturarla han sido absueltos cómo esclarecemos esos hechos cómo se esclarecen esas circunstancias

nos dice el señor alfonso que hay una escenificación para la derrota

y me pregunta es no estará ahí señor alfonso

pero entiendo que los promotores nunca han tenido ni han empleado esos términos ni han tenido esa voluntad a la hora de hacer la convocatoria

y cuando se pretende ridiculizar se corre el riesgo de acabar haciendo el ridículo la forma de expresarse de la sociedad civil que es la verdadera protagonista

por medio de concentraciones lo más masivas y lo más plurales posibles creo que va a haber otros actos

pero que no van a ser ni tan amplios ni van a ser tan plurales los organizadores de baiona han dicho que este acto va a conllevar también

todas las víctimas creo que se han intentado desprestigiar a estos

a la sociedad civil involucrada y los quiero reivindicar precisamente por los riesgos que han decidido asumir por su aportación también por su inspiración y reclamo y solicito seamos nosotros y nosotras también